gracias señora presidenta buenos días a todos después de haber analizado el dictamen sujeto a votación lamentamos profundamente que el pacto al que han llegado pnv pse

no venga a solucionar ninguno de los problemas existentes en el tribunal vasco de cuentas que eran objeto además de modificación urgente después de la desvergüenza del caso bilbao

vista su actual norma reguladora seguirá sin estar garantizada gracias a los intereses partidistas y los juegos de poder de la antigua política que ustedes representan

o alguna otra causa menor de abstención o recusación pero no han asegurado la independencia del organismo que sigue estando controlado directamente por este parlamento

propias además de su vieja política así pues ya sabemos que los diputados de este parlamento pueden salir un día de aquí para colocarse al día siguiente en una institución

asegurándose un porvenir a costa del esfuerzo y bolsillo de todos los vascos y no miro a nadie señores del pnv

sin perjuicio de todo lo anterior y aunque sentimos que todos ustedes existan para cambiar nada no nos sorprende en absoluto este pacto bien es sabido los repartos de cargos y sus gustos por las

para controlar las instituciones del estado con el fin de desviar silenciar o influir en decisiones que pudieran afectarles cómo les va la negociación para colocar a sus amigotes al frente del consejo general del poder judicial piensa el partido popular seguir claudicando ante el partido ni socialista ni obrero ni español y el partido nacionalista vasco en vez de dar un paso al frente para defender los intereses de todos los vascos y renunciar de una vez por todas a la corruptela

política que todos ustedes representan por cierto

para contaminar con su ideología de género y su agenda progre la propia institución así plantean un simple y vergonzoso reparto

les hago una pregunta ese reparto equilibrado por ejemplo del cincuenta por ciento ya que ustedes solo hablan de equilibrio y no de equidad no estaría asegurando que haya

me explico si del total de siete miembros que componen el tribunal se diera el caso de que los siete miembros que componen el tribunal las mejores candidatas fueran las mujeres expulsarían ustedes a tres o cuatro mujeres

lo dicho la imparcialidad del tribunal vasco de cuentas es fundamental para que no se dilapide el dinero de todos los vascos y esta necesidad se ha quedado nuevamente olvidada de los siete puestos del tribunal cinco para pnv y psoe

ese puesto se lo digo yo amoldarse a los intereses de los partidos que sustentan al gobierno y eso saben ustedes que no es favorable para la ciudadanía vasca muchas gracias

muchas gracias señora presidenta señorías se presenta hoy ante el pleno de esta cámara el dictamen de la comisión después de que la ponencia lo haya realizado

llevamos un año de trabajo con esta ley finalmente yo me congratulo de decir que hemos alcanzado un acuerdo en este caso con los grupos del gobierno

señorías una sociedad avanzada una sociedad crítica y transparente precisa de organismos de control

en este sentido a principios de esta legislatura se presentaron ante este parlamento ante esta cámara dos proposiciones por parte de grupos parlamentarios dos proposiciones para reformar la ley del tribunal vasco de cuentas públicas ningún otro grupo lo hizo

una la hizo el grupo eh bildu que presentó una proposición de reforma que incluía era solamente un párrafo en la que decía que los miembros del tribunal vasco de cuentas públicas tenían que ser elegidos

al peso que tenía cada grupo político en el parlamento nosotros nuestro grupo el grupo pp ciudadanos presentamos otro texto más extenso que modificaba una serie de artículos de la vigente ley en esa modificación en esa propuesta que incluimos nosotros una serie de propuestas de modernización particularmente de esta institución discreta pero que es importante en nuestro

el dictamen que se somete hoy a consideración de sus señorías ha sido fruto del acuerdo del consenso

interesantes aportaciones aunque parece que este grupo ha presentado un voto particular pero interesantes aportaciones del grupo elkarrekin podemos

a lo mejor que ver con lo que es el tribunal de cuentas pero sí eran expertos en materia por ejemplo de políticas y de otras instituciones para prevención de la corrupción lo cual sin duda yo creo que ha ayudado a enriquecer todas las aportaciones que se han podido hacer

es una pena que el grupo mixto que el grupo parlamentario representado por la señora amaia grisaleña pues no haya participado ni en los debates de la comisión ni en la ponencia lo cual sin duda también yo creo que habría enriquecido

de este producto que insisto ha sido ha sido y es globalmente positivo primero a qué acuerdos se han llegado y por tanto cuáles son los cambios

un aumento de la transparencia en segundo lugar un aumento de la independencia de los consejeros y de su idoneidad y en tercer lugar un aumento de la imparcialidad del órgano primero un aumento de la transparencia se han incluido una serie de medidas destinadas a

legal de publicar una serie de información relevante en la página de la transparencia incluso

una parte reglamentaria que incluía una parte también sancionadora en caso de que algún organismo se negara también a participar o a colaborar con él se ha en segundo lugar desarrollado se han incluido también una serie de medidas

de la necesidad de elegir a la terna o al conjunto de consejeros por mayoría absoluta a tener que hacerlo a partir de ahora

que yo creo que eso garantiza en gran medida el que los grupos parlamentarios tengamos la obligación de proponer personas realmente idóneas realmente capaces realmente independientes para ocupar y para realizar estas actividades se aumenta también hasta los doce años la necesidad de experiencia previa en materias que estén relacionadas con

y en el caso de la imparcialidad del órgano se codifican es decir se incluyen en la propia ley las causas de abstención y recusación de los consejeros

y por tanto se incluyen una serie de situaciones en las que por conflicto de intereses

tendría que abstenerse de participar en la cuestión que le afecte en segundo lugar autocrítica

pues hombre lógicamente fruto del acuerdo del consenso nuestro grupo tiene seis escaños en esta cámara de setenta y cinco y lógicamente hemos tenido

hemos digamos dialogado durante un año de manera muy fructífera y hemos persuadido hemos conseguido persuadir y agradezco además la colaboración y la buena disposición de los portavoces

de que por lo menos llegásemos a un acuerdo esencial uno de ellos era el aumento a la mayoría de los tres quintos qué nos ha faltado

haber convertido al tribunal vasco de cuentas públicas en el modelo a seguir

por ser el más avanzado de todas las estructuras y de todos los organismos de control que existan tanto en españa como en europa qué no ha sido posible incluir que nos habría gustado por ejemplo el periodo de carencia de dos años al que también se ha hecho referencia anteriormente o incluso un año antes de que personas que han ejercido cargos públicos

la verdad es que seremos el único órgano junto con baleares que todavía no ha incluido

esta inelegibilidad en segundo lugar también nos habría gustado incluir por ejemplo la fiscalización del propio parlamento la fiscalización del propio parlamento de no

las cuentas internas lo que es el funcionamiento los más de treinta millónes de euros que si mal no recuerdo es el presupuesto de este órgano de este parlamento hay ya comunidades autónomas en españa que han incluido esta posibilidad creo que está castilla y león valencia

podría salvar esta ausencia que tiene entre otras cuestiones la ley en todo caso finalmente la valoración es que se trata de un acuerdo positivo es un acuerdo que produce yo creo que un consenso bastante amplio y bastante razonable incluso insisto se han admitido

que propuso el grupo elkarrekin podemos y yo creo que a pesar de que evidentemente es una reforma que tiene limitaciones y que a nosotros nos hubiera gustado ir más lejos pero es una reforma que supone un gran paso adelante y que supone un paso en la buena dirección como digo

pero yo creo que en todo caso el saldo final

un tribunal que forzosamente tendrá que incluir personas consejeros con mayor idoneidad más capaces más independientes

gracias señora presidenta señor lehendakari señores consejeros y consejeras

función del tribunal de cuentas es el control de la actividad económico

respeta los principios de legalidad eficiencia y economía el tribunal vasco de cuentas públicas debe ejercer un control externo de la administración su función jurisdiccional es el enjuiciamiento a la responsabilidad en que incurren quienes se encargan de manejar los bienes caudales y efectos públicos

en primer lugar nos toca a nosotros regularlo sin embargo nuestro grupo parlamentario considera que la modificación de la ley del tribunal vasco de cuentas públicas que hoy

tenemos a bien debatir no alcanza digamos los parámetros que a nuestro grupo parlamentario

apoyarla creemos que se ha perdido una oportunidad histórica para que efectivamente como decía el señor gordillo

en la cuestión creemos que el tema lo merecía con esta modificación del tribunal vasco de cuentas públicas tendríamos que hacer un ejercicio de retrotraernos al dos mil quince cuando el entonces diputado general de bizkaia josé luis bilbao fue elegido presidente del tribunal vasco de cuentas públicas

hoy en día la verdad es que para nuestro grupo parlamentario la transparencia y la credibilidad de nuestras instituciones es fundamental y

en lo que respecta al tribunal vasco de cuentas públicas

con esta modificación esta circunstancia podrá volver a repetirse y por tanto nos parece que es una carencia evidente en la tramitación de esta modificación y vuelvo a decir por tanto no podremos apoyarla y uno de los elementos que hubiese podido evitar que fuese así hubiese sido el elemento de la carencia que

no es algo excepcional sino que prácticamente en todas las comunidades autónomas a día de hoy ya está regulada la figura de la recusación y de la abstención

es un paso adelante pero en nuestra opinión lo único que evidencia es que se tenía razón a la hora de querer establecer

es un mecanismo que viene a sustituir la carencia a razón de reconocer implícitamente

que eran necesarias algunas fórmulas para evitar en este caso lo que a nuestro entender era bastante irregular o anormal que era que josé luis bilbao fuese presidente del tribunal vasco de cuentas públicas pero

nos parece que la recusación y la abstención son figuras en este caso insuficientes porque quedan al albur de la voluntad de la persona concreta que se abstuviera o en su caso también de la capacidad de recusar al vocal implicado por parte de la institución

sí que es cierto que hay alguno de los elementos que

que han sido incluidas por ejemplo el hecho de que se audite o se pase a examen digamos la actividad del tribunal vasco de cuentas públicas por parte de un organismo externo ya fuese por parte del tribunal

ofrece transparencia que antes no había y también un control externo que a nuestro entender tiene un carácter más independiente

nos parecía crucial que también se ha mencionado ya que era el control por parte del tribunal vasco de cuentas públicas del parlamento vasco pero no se ha dicho

que hay otro elemento que queda fuera y era que

la candidatura a la presidencia del tribunal vasco de cuentas públicas no va a presentarse en comisión de economía y hacienda motivando su proyecto y

con un cierto grado de transparencia poder adoptar la decisión de apoyar o no la candidatura que corresponda

adecuada en el trámite de elección de la presidencia del tribunal vasco de cuentas públicas sí reconocemos el avance que supone el hecho de que pasemos

en cuanto a la elección de la presidencia del tribunal vasco de cuentas públicas y del resto de sus miembros

hasta la fecha la mayoría simple a nuestro entender no permitía digamos que hubiese una mayoría amplia de esta cámara

de este órgano o de la composición de este órgano en este sentido sí que valoramos que es positivo

no desde luego consideramos que hubiese sido una fórmula la proporcionalidad que en este caso la planteaba como fórmula eh bildu porque creemos que es un mecanismo que además los comparecientes que han participado en el trámite

de esta proposición de ley han dicho básicamente la mayoría que no era la vía adecuada sino que la mayoría cualificada permite que haya un mayor consenso entre diferentes fuerzas políticas tampoco nos parecía que hubiese sido un modelo que se hubiese

entre los propios corporativos o entre los propios sectores profesionales en la materia sí nos parece que bueno pues también es positivo el hecho de que se plantee que

de cualificación de doce años en este caso de reconocida experiencia para el acceso a determinados puestos pero ya digo a nosotros el hecho

nos parecía una línea roja y así se lo expresamos a los grupos parlamentarios

porque con esta modificación puede volver a reproducirse el hecho de que josé luis bilbao o cualquier otro acceda a la presidencia del tribunal vasco de cuentas públicas

para la institución también planteamos a través de alguna de las enmiendas

de transparencia en relación con la actividad del tribunal vasco de cuentas públicas que en este caso pues no ha sido posible sumar

que hoy viene a esta cámara pero vuelvo a decir que más allá de ciertos avances tímidos en nuestra opinión respecto a las garantías en la recusación o en la abstención o en su caso en la perspectiva de género que también nos parece un elemento relevante y que entiendo que se mencionará creemos

de la ley del tribunal vasco de cuentas públicas hace que nuestro grupo parlamentario no pueda apoyar

este texto articulado y la verdad es que

una amplia mayoría de grupos es decir que prácticamente

que es algo muy generalizado en el resto de normativas

de cuentas públicas no debiese haber supuesto un problema pero finalmente parece que ha sido así

no nos posicionaremos favorablemente al dictamen eskerrik asko eskerrik asko soto jauna euskal sozialistak

izendatu zuten epaitegi horretako kide el otro día preguntándole a usted señor lehendakari sobre las reiteradas puertas giratorias que se dan en este país le indicaba que estas son

internivel y multidireccionales que no todas llevan a consejos de administración de empresa privada

serio sincero con una perspectiva amplia para transitar hacia un órgano de máxima independencia transparencia y objetividad un órgano designado por el parlamento sí

sí pero alejado de los intereses partidistas nuestra propuesta

sin ningún cambio con respecto a aquella ocasión no presentamos ni cambiamos un ápice pero al menos

cierta proporcionalidad con la representación democrática de la cámara

intereses que nada tienen que ver con la transparencia y la independencia y lo hacen además señoras y señores del partido nacionalista vasco y partido socialista de euskadi de la mano del partido popular que en este ámbito precisamente en buenas prácticas y buen hacer no son precisamente ejemplares ustedes van a poder nombrar al presidente o esperemos presidenta del tribunal vasco de cuentas públicas

sin además requisitos o experiencia profesional en la auditoría

porque no se va a exigir tampoco en base a la ley que hayan tenido una experiencia profesional como técnico auditor o como auditora de un órgano de estas características hemos

dependiente del ministerio de hacienda en el cual son personas funcionarias

a la presidencia por ejemplo de esta oficina o también tenemos aquí en nuestro país la cámara de comptos de nafarroa donde la señora presidenta asun olaechea es

recorrido profesional en la materia fue técnica auditora

a ser presidenta pero eso con esta ley no se va a exigir aquí con esta legislación se va a poder nombrar a quien convenga

se ha recogido incluso permitiendo puertas y digo a quien convenga porque se van a permitir

puertas giratorias como la que protagonizó el señor josé luis bilbao en la cabeza hace seis años porque esta ley que hoy aquí se va a aprobar

lo permite una cosa son las palabras y los discursos pero aquí está el texto de la ley y precisamente que se vuelva a repetir lo que sucedió hace seis años se puede dar con la ley que hoy se va aquí quieren hacer parecer que se dan cambios para apenas cambiar nada eta beraz gertatu da ponentziatik pasa diren adituak

egun on lehendakari jauna sailburuok jaun andreok egun on guztioi desde el partido nacionalista vasco siempre hemos defendido que la creación de este tribunal supuso hace más de treinta años un importantísimo paso adelante en el desarrollo del autogobierno de euskadi y

hemos creído relevante esta modificación de la ley que regula el funcionamiento del tribunal porque una ley que tiene a su espalda todos estos años de vigencia desde mil novecientos ochenta y ocho nada más y nada menos necesita

sino de reforzar y apuntalar sus valores y principios y sobre todo con el fin de mejorar el funcionamiento

estos y no otros debieran ser los motivos para plantear una reforma

tras su paso por la ponencia y comisión correspondiente durante un trabajo

que sirvió a mi grupo para introducir una serie de cambios que entendemos son beneficiosos y cuáles son estas mejoras

las más relevantes primero aumentar las garantías en cuanto a la pluralidad de la

requiriendo para su elección consensos más fuertes entre las diferentes fuerzas con representación en la cámara y así la propuesta el dictamen recoge que las y los

a la mayoría absoluta que consta hoy en día

más que en la actualidad y además los mandatos tendrán una duración de seis años pero se fija un límite

de las y los miembros de este tribunal y en adición a las ya recogidas

en asociaciones o fundaciones que tengan que rendir cuentas ante este tribunal y además

mientras las y los miembros se encuentran en activo pues no podrán desempeñar otros cargos públicos y

actuar en representación de un partido político o sindicato y en estos puntos que podría seguir pero que los portavoces que me han precedido ya han expuesto en más detalle en estos puntos que resumidamente he mencionado

consenso paridad imparcialidad

en los que hemos trabajado y son aspectos vitales para el funcionamiento y el correcto funcionamiento del estado de derecho y qué compartimos o qué textos y trabajo hemos compartido con los demás grupos y que hoy están en este dictamen pues en aras a perfeccionar este organismo

que hoy no van a apoyar este dictamen una pena pero que estimamos eran aportaciones positivas y que se han incluido sin perjuicio de que no estaban en nuestras propuestas originales y como ejemplo

de la obligatoriedad de revisar las cuentas del tribunal por una auditoría externa u

otros grupos comparten con nosotros la mayoría cualificada es algo que compartimos todos los grupos de esta cámara y que está en línea con la opinión de todos los expertos que han pasado

de la ponencia mejora que está avalado por todos los grupos

este año pues parece que no le ha resultado relevante o interesante aportar ninguna enmienda y

también se incluyen otras mejoras novedosas respecto a la de otros grupos y que hemos propuesto nosotros como son la paridad o el refuerzo en las causas de abstención

conjunto en el que hemos compartido nuestras propuestas compartidas con otros grupos incluso incluyendo en este dictamen propuestas

sintiéndolo mucho no apoyarán este dictamen pero aun así y

las intervenciones de los portavoces de eh bildu y podemos pues van a preferir

y yo me pregunto por qué porque prefieren establecer líneas rojas en la carencia y en la proporcionalidad no veo más

eh bildu como decía antes quienes se limitan a copiar su iniciativa del dos mil quince y sin incorporar incluso sus propias enmiendas del diecisiete

quienes nos exigen a los demás incorporar todas las propuestas de todas y todos los expertos

relativa a la proporcionalidad de la cámara no mejora la objetividad del tribunal

y siguen defendiendo su lugar en el tribunal en proporción a su representatividad

cómo pretenden buscar la objetividad y neutralidad de los y las miembros cuando a su vez ustedes eh bildu proponen cupos de proporcionalidad

de qué estamos hablando si buscan la objetividad de este tribunal

que la combinación de ambos objetivos según su versión sería una clara contradicción por otro lado tanto elkarrekin podemos como eh bildu no apoyan este texto por el hecho de no incluir su propuesta que haya una especie de cuarentena de ciertos años para acceder a cargos de este tribunal no sé por qué aplican

el principio de sospecha y no el de inocencia por qué tienen esa desconfianza previa cuando se trata de personas que han cumplido escrupulosamente con todos los requisitos de acceso que marca la legislación y que han defendido con honradez y profesionalidad el interés general

por lo que hacen o no hacen pues al tribunal vasco de cuentas también juzguemos sí pero juzguemos comportamientos y actuaciones

ustedes solo ven un cartel el de la adscripción política y claro si es el del partido nacionalista vasco pues directamente no es de fiar lo de menos es si lo hacen bien o lo hacen mal

y más una o un político o cargo público

meterse debajo de la mesa y no volver a salir porque no es de fiar ustedes hoy aquí han vuelto a sacar

y en esta vía de la acusación yo hoy tenía que haber sacado salido con una camiseta aquí de la bilbao bilbao porque vuelta a citar aquí con juan josé luis bilbao señor estarrona no sé qué necesidad

estamos absolutamente seguros de que todas y todos han defendido el interés general y de que lo han hecho con independencia y profesionalidad lo que hay que hacer es garantizar que las personas elegidas no puedan auditar ni votar asuntos que afecten a la institución de la que proceden

reforzando esas causas de abstención y causas de recusación creemos que ese es el camino y además no nos tenemos que olvidar que a esta modificación de la ley que planteamos se les suman las normas vinculadas al código ético

cargos públicos y que como ustedes saben escrupulosamente deben

quienes ostentan estos cargos cumplen con los requisitos requeridos no son

proposición de ley que se somete hoy a consideración de esta cámara es un acuerdo que es positivo que en el que los grupos que hemos participado de manera activa

muchísimo la regulación anterior se pasa de una mayoría absoluta para designar a los

que tendrá que haber un consenso amplio en esta cámara para la designación de los consejeros se incluyen además en la ley una serie de medidas los supuestos de incompatibilidad etcétera yo creo que eso es muy positivo que se podría haber mejorado la ley y se podrían haber incluido lo han dicho el señor estarrona el señor soto

una carencia efectivamente lo he dicho en la autocrítica que yo también me hago lo que pasa es que en aras de encontrar un consenso y puntos de encuentro y evidentemente en un parlamento donde para aprobar leyes pues hay una mayoría también absoluta de los grupos que sustentan al gobierno pues yo creo que el acuerdo no obstante es muy positivo me extraña un poco lo que ha dicho el señor estarrona porque él también ha hecho autocrítica porque hombre la propuesta que presentó su grupo era un párrafo

estableciendo todo ese tipo de cosas que por cierto iba luego nuestra propuesta yo sí valoro en cambio positivamente

sobre todo en la comisión donde el propuso una serie de expertos que vinieron a dar la opinión más de la mitad de los expertos que propuso

que ver directamente con lo que era la función del tribunal de cuentas pero bueno no obstante sus consideraciones han sido interesantes

para avanzar y para dar un paso adelante y para mejorar la regulación lo contrario mantener la regulación actual que es lo que implicaría el sentido de su voto pues yo creo que

independencia de este tribunal vasco de cuentas públicas yo por eso les animo sobre todo al grupo elkarrekin podemos que hombre que si no votan a favor al menos se abstengan para reflejar un poco yo creo un consenso relativamente amplio

no nos vamos a abstener vamos a ver sí que creo que había dos elementos fundamentales que

de esta proposición de ley que por un lado era la elección de la composición del tribunal vasco de cuentas públicas pasara a la mayoría cualificada o en su caso a una

yo creo que fruto de las comparecencias de los diferentes expertos ha quedado en evidencia y ha quedado bastante

nosotros creemos que incluso al margen de formar parte o no de los acuerdos cuando corresponda elegir la composición del tribunal vasco de cuentas públicas nos parece que es la mayoría cualificada una forma mucho más adecuada que garantiza más la objetividad y también la pluralidad

en el espacio del tribunal vasco de cuentas públicas bien salvada esa cuestión que podría haber motivado nuestro acuerdo estaba el otro elemento que sí a nosotros nos parece bastante relevante y bastante importante y entiendo que al partido popular ciudadanos en un

proposición figuraba y de hecho si nuestro planteamiento es votar en contra es precisamente por una enmienda de supresión del partido socialista y el pnv a su proposición de ley

la carencia y usted lo ha dicho es un elemento de garantía que está establecido en todos los tribunales de cuentas salvo el balear

por la que no figura el elemento de la carencia es uno y es muy simple que es

establecer la carencia como un elemento de garantía en esta tramitación de ley es asumir

y por eso es por lo que no figura el elemento de la carencia si no seguro que figuraría estamos convencidos de que figuraría porque tampoco hay razones de peso y motivadas para no establecer el elemento de la carencia ha salido aquí la portavoz del partido nacionalista vasco y tampoco ha dicho

la abstención junto con nuevos elementos de incompatibilidad más la normativa que ya existe respecto a conflictos de intereses garantiza

porque por esa regla de tres pues en fin vayamos a hacer un ejercicio comparado y en el resto de tribunales de cuentas por qué figura entonces el elemento de la carencia pues como una garantía previa no como una garantía a posteriori una vez elegidos los miembros

para no posicionarnos a favor en cualquier caso sí que es cierto y en este sentido no puedo dejar pasar mi última intervención sin decirlo que la actitud

de nuestro grupo parlamentario más allá de nuestro posicionamiento ha sido muy positiva nos ha tendido la mano constantemente y todo lo que ha tenido que ver con un enriquecimiento del texto

adelante en la medida de las posibilidades y de los consensos que se pudiesen generar por parte de su grupo parlamentario y del partido socialista de euskadi pues bueno se han propiciado y han sido así es verdad que luego ha habido otros elementos que han quedado fuera

sí que quiero hacer ese reconocimiento antes de irme de la tribuna y sí que un elemento a mí

hipocresía política que la señora berrojalbiz lo decía al principio de la intervención

no sé quiero decir yo no creo que estemos mantenido una posición de hipocresía política en ningún caso con nuestra posición creo que

siempre ha sido una constante por nuestra parte y por tanto que el hecho de que ahora se pueda volver a repetir ese caso motive nuestro posicionamiento en contra creo que es coherente no creo que

en ningún caso otros sí tendrán que justificar la razón por la cual en su momento lo criticaban y era motivo para no formar parte de la modificación del articulado

de la ley del tribunal vasco de cuentas públicas y en cambio ahora lo aceptan eso es lo que otros tendrán que preguntarse y para mí eso sí es un ejercicio de hipocresía política

andrea ya he explicado en la primera intervención el porqué de presentar idénticamente sin cambiar un ápice

poder mejorar la ley pero ya vimos la actitud de los grupos que sostienen al gobierno según esa ponencia también iba desarrollándose una actitud de cambiar apenas nada

una serie de comparecencias de todos los ámbitos del ámbito de euskal herria también del estado y europeo y decía el señor gordillo que la mitad de ellas pues igual no tenían nada que ver bueno yo creo que todas las oficinas antifraude que han pasado

nos han enseñado muy mucho de cómo se deben elegir

señora berrojalbiz la proporcionalidad democrática de una cámara como es la del parlamento

cómo se puede tender hacia la independencia de los y las miembros que ocupan dichos órganos y hemos tenido

el respeto a la proporcionalidad no tiene por qué estar reñido con la independencia a la hora de proponer dichos

se mejora se mejora en una cosa de pasar de la mayoría

a los tres quintos pero al igual que yo reconozco que eso es una mejora

y por qué no se ha hecho eso hagan números de los acuerdos que necesitaríamos con la representatividad actual y entenderán el porqué de este acuerdo con el partido popular

y respecto a la aportación que se hace en términos de igualdad y en términos de género en la cuestión de género

es decir que en la presentación de las candidaturas que haya un equilibrio en la presentación que no en la elección

miembros del tribunal vasco de cuentas públicas a la hora de presentar haya un equilibrio pero luego en la elección ya es otra cosa y además ustedes lo hacen como

diciendo lo que estaría bien que se diese ese equilibrio pero no establecen

esa igualdad sea efectiva y real a la hora de la elección de las personas que vayan a conformar

dicho órgano y luego pues bueno se ha hablado aquí ya del periodo de carencia y el

es verdad que se establecen una serie de causas de abstenciones y de conflicto de intereses pero para mí la pregunta

otra vez un caso como el del señor josé luis bilbao con la ley que se aprueba hoy aquí sí se puede dar se puede dar o haciendo una pregunta también con el punto anterior con el tema de género e igualdad

sí se puede dar por lo tanto una cosa son las palabras y los discursos y luego está el texto de la ley y existe un consenso generalizado y lo hemos ido escuchando a lo largo de todas las comparecencias en el ámbito internacional al establecer los principios respecto al sujeto auditor tal y como nos han ido explicando en las comparecencias como decía

y en cuanto a formación técnica lo dicho no se recoge la necesidad de una experiencia profesional como técnico auditor o como auditor y luego está

de mano del partido popular hoy aquí para el tribunal vasco de cuentas públicas lo siento pero no no atiende a estos principios generales del ámbito

señor estarrona hoy eh bildu eso sí indicará que no es ambicioso ni en la paridad ni en las mayorías

nosotros hemos propuesto lo que también por derecho comparado hemos considerado que mejora el funcionamiento de esta ley pero que me lo diga usted señor estarrona cuando no ha propuesto ninguna de estas mejoras por vía de enmiendas pues me parece

curioso nuestro grupo como decía

por las funciones del tribunal eta nire ustez eh bilduk eta

ya saben ustedes que y tal y como queda reflejado en el dictamen que hemos mejorado como decía en euskera la imparcialidad la transparencia y la objetividad mayorías cualificadas de tres barra cinco refuerzos en las causas de abstención recusación o incompatibilidad

mejoras que hemos propuesto partido nacionalista vasco socialistas vascos y que han sido mejoradas con las propuestas del grupo popular vasco ciudadanos incorporando algunas mejoras

no había propuesta que incorporar y como decía antes a este dictamen y a esta mejora que traerá esta ley

y una pena que no quieran unirse a esta ola viendo la clara mejora de esta ley tendente a mejorar lo que estos grupos y los demás grupos siempre han reclamado no yo una vez más

y que no se queden en un interesado debate sobre la credibilidad y a su entender falta de confianza de quienes trabajan en este tribunal porque sepan que todas estas turbulencias artificiales solo dañan la imagen de un órgano que necesita otro clima y no el que

buenos días aprovecho este tiempo de explicación de voto para manifestar que los socialistas vascos nos alegramos de la aprobación de esta ley y de su reforma puesto que afecta a uno de los organismos que dependen de este parlamento que rinden cuentas ante él y ante los ciudadanos y porque con esta modificación contribuimos actualizar

una ley que cuenta ya con treinta y dos años de vida pero sin perder la flexibilidad y la capacidad de autoorganización que ha acompañado a las actuaciones del tribunal en este sentido quiero también aprovechar para transmitir que la razonabilidad

independencia esa actitud y en definitiva la calidad de los informes del tribunal está debidamente garantizada por la solvencia técnica de sus trabajadores auditores letrados y consejeros y por los sistemas de trabajo

estamos hablando del tribunal de cuentas de quien está encargado de fiscalizar a las administraciones públicas

en la necesidad de reforzar las condiciones de imparcialidad de experiencia y de conocimiento técnico de sus miembros esa es la razón por la que destacamos como aspectos muy positivos en la modificación de esta ley y que ya se han destacado previamente el refuerzo

para elegir a las y los miembros del tribunal vasco de cuentas públicas el refuerzo de la transparencia la limitación a una renovación

ampliar el perfil de los candidatos pero también una mayor exigencia de experiencia la necesidad de una designación equilibrada

la elaboración de un reglamento interno y el refuerzo de los supuestos de incompatibilidad y abstención

por todo ello nos alegramos mucho del trabajo y del consenso en torno a todas estas mejoras porque entendemos que con estas modificaciones contribuimos a generar

de los órganos fiscalizadores de las cuentas públicas nada más muchas gracias eskerrik asko

para poder plantear medidas que respondan a las necesidades actuales en salud mental de la ciudadanía are gehiago

por cierto un estudio subvencionado por el departamento de igualdad justicia y políticas sociales y en su presentación además había representantes tanto del departamento de salud como del departamento de políticas sociales alabando el estudio

análisis porque aquí se dice que no es necesario hacer un diagnóstico pero los agentes y los colectivos que día a día trabajan en salud mental lo ven y es más van más allá lo hacen viniendo a cubrir una necesidad que no se cubre desde el departamento y

y bueno y luego aplicar las recomendaciones que nos dan eso también es importante guk gure proposamenean jasotzen dugu egiten dena

porque este estudio como otros antes pues resulta ser revelador y si no lo han leído les invito a hacerlo

pero yo subrayaría las que han subrayado desde la propia federación dos ideas los problemas en salud mental se han incrementado en la infancia la adolescencia la juventud se han incrementado son el colectivo que mayor impacto psicológico han sufrido en la pandemia

algo muy preocupante entonces algo no estaremos haciendo bien para que estos sean los resultados porque no estamos hablando de una realidad que disminuya estamos hablando de una realidad

por esto no queremos hacer análisis porque no nos van a gustar los resultados

hay que crear recursos sociosanitarios que prácticamente nos dicen que no existen y hay que aumentar la presencia de profesionales de salud en el sistema salud mental perdón en el sistema horiek proposamen batzuk

en estos momentos pensamos que existen datos objetivos para afirmar que la salud mental ha empeorado en nuestra comunidad autónoma y por eso registrábamos el pasado mes de septiembre

no de ley en este sentido para incidir en este asunto que como bien se ha dicho y nosotros compartimos debería ocupar un lugar central en las políticas del gobierno vasco en los próximos tiempos en los próximos años pensamos que existen datos

ha empeorado de una manera importante en euskadi en los últimos años y lógicamente de manera preocupante con la pandemia que aun vivimos según diferentes estudios realizados en la comunidad autónoma del país vasco los niveles de estrés ansiedad depresión que ha traído la pandemia

pero además pensamos que tenemos datos suficientes para identificar a aquellos sectores y colectivos que mayor afección de problemas de salud mental están sufriendo se viene dando

de las demencias abuso del alcohol y otras adicciones y trastornos

a los que en nuestra opinión y en opinión de muchos profesionales a los que hemos podido escuchar se van a sumar nuevos casos nuevas patologías en el medio plazo

suicidas por tanto nosotros consideramos esencial reforzar el marco asistencial y adoptar acciones específicas

por eso desde elkarrekin podemos e izquierda unida proponemos con esta proposición no de ley

de la sanidad pública a la salud mental y lo hacemos lo queríamos hacer en dos sentidos concretos en primer lugar planteamos un reforzamiento de manera general de las políticas de atención a la salud mental lo que requiere obviamente de un aumento de profesionales y de un mayor presupuesto dentro de nuestro sistema público pero también pensamos que requiere de un mejor conocimiento y de una mejor evaluación de la atención existente en estos momentos para ser más eficaces en ese refuerzo pensamos que no se trata solo de aumentar presupuesto sino de aumentar presupuesto y profesionales para garantizar una adecuada

y en segundo lugar lo planteamos dirigiendo de manera focalizada en aquellos sectores y colectivos que ya sabemos que son los que con mayor dureza están sufriendo ese aumento de los problemas de salud mental las personas más afectadas por el sufrimiento psicológico en la población general las mujeres y los jóvenes menores de veinticinco años así incluiríamos aquí al personal sanitario del sector de cuidados y a la comunidad educativa al verse obligados a realizar un trabajo de adaptación drástico y urgente

la sanidad pública tiene que tener en cuenta en nuestra opinión en estos momentos no solo el impacto adicional al que me he referido que han supuesto los nuevos riesgos derivados de la pandemia el confinamiento distanciamiento social falta de socialización la frustración

sino también los efectos socioeconómicos que han afectado sobre todo a las personas con rentas más bajas y a las personas en grave situación

social la pandemia en nuestra opinión ha puesto de manifiesto las debilidades de la gestión en salud pública en euskadi

que yo no voy a discutir seguramente habrá hecho las dos cosas pero nos parece que la obligación en este caso de nuestro grupo es poner de manifiesto las debilidades para intentar corregirlas y poder tener una mejor atención a la salud mental en esta situación complicada

es insuficiente para responder a la creciente demanda de salud mental que existe en estos momentos asimismo la inversión presupuestaria en salud mental respecto a la

ha ido disminuyendo desde el año dos mil once nosotros pensamos que esta cuestión se tiene que revertir es verdad que el presupuesto en salud mental en los últimos años ha aumentado pero es sintomático que dentro del presupuesto de sanidad el porcentaje que representa

esta cuestión en este sentido proponemos una serie de medidas para mejorar la atención a la salud mental como parte del derecho que asiste a la ciudadanía

en un momento donde los problemas de salud mental existentes antes del virus han tomado una nueva y grave dimensión que debe ser atendida desde el sistema público de salud de manera

se trata de medidas encaminadas no solo al aumento de la inversión como decía en salud mental sino sobre todo de medidas encaminadas a focalizar la atención en los sectores y colectivos que mayor atención necesitan en estos momentos medidas en definitiva de refuerzo de nuestro sistema público de salud en el ámbito de la salud mental

de la federación de euskadi de asociaciones de familiares y personas

lo hemos contrastado con la iniciativa que nosotros registrábamos el pasado mes de septiembre y tenemos que decir que pensamos que las propuestas que traemos en nuestra iniciativa van en la dirección de las conclusiones y de las reivindicaciones que de

y por eso pensamos que hacemos una propuesta que va en la buena

priorizar la salud mental garantizando la igualdad universalidad y gratuidad de acceso a las prestaciones y servicios de salud mental públicos para toda la ciudadanía y en especial para la población de niños niñas adolescentes jóvenes

y mujeres con el desarrollo de una atención temprana que evite el desarrollo posterior de patologías

y diversidad sexual de manera integral en el diseño de las políticas y de las estrategias en torno a la salud mental sabemos que en estos momentos

con estados de salud mental similares según estudios de la upv los diagnósticos de depresión y ansiedad son más frecuentes en las mujeres y con estados de salud mental

por lo tanto estas cuestiones pensamos que se deben corregir sabemos que existe una clara relación entre el nivel de desigualdad de género en la sociedad y las desigualdades de género en salud mental planteamos también una cuestión que nos parece importante garantizar el derecho a la autonomía de las personas con problemas de salud mental

nos dicen quienes están analizando estas cuestiones que faltan recursos de apoyo para promover la emancipación de estas personas faltan recursos residenciales específicos para personas jóvenes con enfermedad mental

de estas personas que existen que existen lo conocemos perfectamente pues parece que son

implementar programas específicos orientados a la prevención y a la promoción de la salud mental en los centros de atención primaria en centros educativos y en los centros sociales priorizando el desarrollo y despliegue del cien por ciento de la cobertura y servicios previstos en la actual cartera de servicios sociales

enfermedad mental no se están desplegando y deben reconocerse programas y servicios para dar respuesta a estas necesidades podríamos

no me va a dar tiempo así que sí que quería simplemente terminar con una cuestión

hayamos traído esta cuestión al parlamento vasco porque esta cuestión en estos momentos es una cuestión muy importante que se debe abordar nuestro grupo ha intentado negociar con otros grupos hemos intentado llegar a un acuerdo con los grupos que sostienen al gobierno

de acercamiento pero también en ese esfuerzo o en ese ejercicio hemos contrastado los puntos que teníamos en común que los tenemos hay coincidencias pero también aquellas divergencias que tenemos en estos momentos por eso nosotros

no va a salir vamos a seguir trayendo iniciativas

porque pensamos que en estos momentos el gobierno vasco tiene que prestarle más atención a la cuestión de la salud mental que muchas veces es una cuestión que pasa silenciosa

y contundente afección en nuestra sociedad y en estos momentos una grave una situación de gravedad diría yo que se ha elevado y que por lo tanto requiere un nuevo esfuerzo de por parte en este caso del gobierno

por parte del gobierno y de diferentes departamentos eskerrik asko hernández jauna

impacto importante en la salud mental en la salud emocional y bueno pues han aumentado todos los episodios que tienen que ver

del sueño y sobre todo han tenido un impacto también especial diríamos en las personas más vulnerables como pueden ser los niños y las personas mayores ya en la encuesta

españoles durante la pandemia de la covid elaborado el pasado marzo por el cis

los contagios sobre todo nos estamos refiriendo a las diferentes olas

por muerte contagios el cuarenta y uno por ciento problemas de sueño y el cincuenta y uno casi el cincuenta y dos por ciento se ha sentido cansado o con pocas energías a esto también hay que sumarle no solo las situaciones que tienen que ver con la salud sino la incertidumbre que ha rodeado en relación a las consecuencias o relacionadas con las consecuencias de la pandemia no solo al nivel como decía de la salud sino a nivel también

personas que han podido perder un empleo que han visto su situación laboral también en riesgo y esas son las situaciones precisamente que ahora se pueden estar dando es decir saliendo de la emergencia sanitaria sí que es cierto que

repuntes en la comunidad autónoma del país vasco pero como bien ayer se nos decía por parte del

que eso no conlleva que podamos estar inmersos en una quinta ola

sí que es cierto que estas situaciones de incertidumbre siguen estando ahí

los ciudadanos lo siguen percibiendo como tales y sobre todo

y del empleo es cierto que fedeafes la

ha hecho a lo largo de no solo de la pandemia reflexiones

estudio del año dos mil diecinueve hablaba sobre

la oferta de recursos sociosanitarios en la comunidad autónoma del país vasco hablamos antes justo de estallar el escenario de la pandemia que hemos

en ese sentido nosotros tenemos que decir que hemos presentado nuestra propia enmienda

aurkeztea bi proposamenei por un lado consideramos importante que se pueda realizar

es algo mucho más puede ser mucho más elaborado en ese sentido nos parecía mejor hablar de un análisis de la situación de la salud emocional y mental no porque no fuera elaborado sino por hacerlo

en un menor tiempo y también que no solo comprenda un diagnóstico de la situación sino que se pueda también

a las medidas que se hayan podido adoptar al impacto de la propia

y también consideramos creo que aquí coincidimos con los dos grupos en la necesidad de reforzar la red de salud mental de la comunidad autónoma del país vasco si introducimos en un segundo punto la necesidad de realizar una evaluación sobre la estrategia de prevención del suicidio en euskadi como todos sabemos aprobada en el dos mil diecinueve

podemos que recoge elkarrekin podemos que recoge este punto en su iniciativa y consideramos oportuno y sobre todo teniendo en cuenta que realizando un análisis en relación a esta estrategia en las que este grupo va a proceder a realizar numerosas preguntas sobre la misma

nos parece que no se ha desarrollado a los ritmos que se tenía que haber desarrollado esta estrategia de prevención del suicidio y por eso viendo que estamos en la mitad

por otra parte en este tema también coincidimos con el grupo podemos hablamos de programas específicos orientados a la prevención y a la promoción de la salud mental en los ámbitos educativo social y sanitario y especialmente en la atención primaria y finalmente algo que sí que

de otra forma hablamos de aumentar la financiación de las plazas de enfermedad mental en los convenios para el gasto sociosanitario

en el número de plazas de los tres territorios históricos y luego sí que hacemos una referencia nuevamente a ampliar los profesionales sanitarios de la salud mental por lo tanto sí que

y sí tengo que decir que en relación a la enmienda presentada por los grupos que apoyan al gobierno a nosotros

un tanto insuficiente creo que además se repite literalmente el texto ya aprobado en junio

o tiene en cuenta mejor dicho la situación o las consecuencias de la pandemia y el impacto en la salud mental y emocional de los ciudadanos vascos porque

ante las consecuencias emocionales y particularmente sobre la salud mental por lo tanto habla de que los servicios de salud mental como decía se mantengan especialmente vigilantes en ese sentido creo que no hace falta decir eso y como siempre con los conocimientos del personal es decir

y lamentamos que el gobierno vasco o los grupos que apoyan al gobierno

merecía ir un poco más allá poder haber realizado ese análisis hablar de reforzar recursos hablar de medidas de prevención y promoción

situaciones de salud mental poder realizar una evaluación de la estrategia del suicidio reforzar plazas que tienen que ver con el ámbito sociosanitario

que había que reforzar y lamentamos que los grupos que apoyan al gobierno no le han visto así besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

presidenta comenzaré diciendo algo que a los socialistas nos parece del todo relevante y es que sin salud mental simplemente no hay salud esta afirmación sirve para identificar la importancia que damos los socialistas a esta cuestión y también es nuestra postura en cualquier institución

son simplemente universales y los socialistas lo tenemos claro promover el bienestar emocional psicológico y social de nuestros ciudadanos y ciudadanas debe ser una prioridad y si es una prioridad esto requiere adecuar nuestra red de salud mental en el caso de euskadi en favor de un modelo asistencial comunitario integral y coordinado entre los programas y dispositivos asistenciales de las osi las redes de salud mental y el sistema sociosanitario y sencillamente

en el gobierno de españa y en el gobierno vasco y si nos referimos a euskadi más concretamente

elaboramos en el mes de agosto de dos mil veinte es decir siendo ya conscientes de la incidencia

y con ello ratificamos hoy nuestra apuesta inequívoca por avanzar en una respuesta ágil integral coordinada y pública de los retos a los que tenemos que hacer frente en lo que se refiere a la salud mental y emocional

pudimos debatir sobre la salud mental en base a una iniciativa de eh bildu una iniciativa que se centraba en el impacto de la pandemia igual

centra todas sus propuestas en la elaboración de ese diagnóstico exhaustivo previo de las consecuencias pandémicas la crisis provocada por la covid es evidente ya lo dijimos en ese debate que ha tenido una incidencia en el bienestar

y esto ya lo señalaron diferentes organismos internacionales desde el principio y realizaron recomendaciones desde ese tiempo tal y como les dijimos en junio contamos con numerosas publicaciones que han estudiado los efectos por ejemplo el informe de investigación sobre las consecuencias psicológicas de la covid diecinueve y el confinamiento realizado por desde la upv ehu en colaboración con otras universidades españolas

les dijimos seguimos considerando que en este aspecto del conocimiento de la realidad de las consecuencias a nivel psicológico hay ya un importante trabajo realizado que por cierto arroja conclusiones coincidentes en todos los ámbitos y esto es así porque no pueden ser de otra manera porque como lo he dicho al principio los condicionantes

son universales otra cosa es que el lugar donde nos haya tocado

la respuesta ante si sucede una patología y eso será en función del nivel de servicios públicos que esa sociedad pueda tener

que centrar y esa era la virtualidad que nosotros vimos en la iniciativa planteada por elkarrekin

más amplio nosotros valoramos más positivamente ese enfoque y es verdad que hicimos una enmienda la misma

pero con una vocación diferente que además se tradujo en que le ofrecimos una enmienda transaccional

garrido muy completa de partida contemplando siete puntos perdón nueve compromisos concretos yo voy a lamentar que tras varios días

transaccional con elkarrekin podemos que yo creo que hubiera planteado un texto bastante más

en un escenario compartido en relación al abordaje de la salud mental y emocional de nuestra ciudadanía tanto en el gobierno de españa como en el gobierno vasco en euskadi comenzamos para no retrotraernos al pleistoceno superior en el año

dimos un paso también de gigante entre todos con la estrategia de prevención del suicidio

entre partido socialista y partido nacionalista vasco este objetivo desarrollándolo ya de actuaciones concretas y de publicaciones como puede ser el propio programa de gobierno donde se recogen estos compromisos el marco estratégico del departamento de salud y más recientemente con la estrategia sociosanitaria que se presentó el pasado viernes y que igual aún no han tenido la oportunidad de estudiar pero es que también estamos trabajando

socio a través del plan nacional de salud mental dirigido por el ministerio de sanidad y en cuya articulación también ha participado el departamento de salud del gobierno vasco por lo tanto creo que a nadie debería sorprenderle que en esto tengamos bastantes

a pesar de que hoy esas coincidencias no puedan ser visibles porque no hemos llegado a esta enmienda transaccional yo creo que era un buen texto

podido alcanzar el acuerdo porque era una enmienda que recogía cuestiones que venimos haciendo tal y como se explicita en aquellos documentos

y otras planteadas para implementar por elkarrekin podemos en su iniciativa original y que coinciden con el planteamiento del desarrollo de este gobierno

y partido nacionalista vasco quiero comentar que recogíamos el compromiso con respecto a la covid diecinueve de mantenernos especialmente vigilantes ante las consecuencias emocionales y los trastornos psiquiátricos

y después abríamos ya el abanico al ámbito general el carácter general para continuar promocionando la salud mental y seguir implementando una actualización continua de las herramientas de respuesta entre ellas desarrollar los programas de salud mental garantizando los principios de igualdad universalidad y gratuidad

subrayar la atención a las necesidades sociosanitarias de colectivos especialmente afectados por ejes de desigualdad o mayor vulnerabilidad social como las poblaciones infanto juveniles

las personas víctimas de discriminación por su orientación sexual y particularmente mujeres con enfermedad mental que sufren violencia de género buscando su mejor atención integral

planteábamos también garantizar el compromiso estratégico del sistema vasco de salud de trabajar con perspectiva de género y atención a la diversidad

coordinar políticas y actuaciones integrales en materia de sensibilización y prevención para erradicar el estigma social asociado a la enfermedad mental

implantando vías para la participación de las personas con trastornos mentales y sus familiares proseguir con el marco de evaluación de la estrategia de prevención del suicidio presentada en dos mil diecinueve e implementar medidas de prevención y detección precoz a través de la coordinación de los diferentes niveles asistenciales sociosanitarios y educativos

de los diferentes ámbitos asistenciales y por último culminar el diseño y desarrollo de una nueva estrategia de salud mental tal y como recogimos en el programa de gobierno una propuesta de enmienda transaccional muy completa y trabajada que por

para promover en todas las instituciones el bienestar emocional psicológico y social de nuestros ciudadanos

a mí hoy no tenemos esta enmienda transaccional tendremos oportunidades de seguir trabajando diferentes acuerdos pero sí quiero trasladar algo que me parece importante porque al menos nos queda la esperanza de saber que aunque hoy no se vote esta enmienda transaccional reflejan los parámetros de trabajo

este departamento de salud del gobierno vasco y por lo tanto es el desarrollo de los ámbitos que recogimos en el acuerdo de gobierno y en las propias estrategias que ya se han ido elaborando por el departamento por lo tanto aun lamentando no tener

hoy me emplazo a seguir trabajando esos puntos coincidimos y que además son naturales porque como se lo he dicho ustedes y nosotros somos socios en el gobierno de españa y estamos con una estrategia de salud mental

elaborando un desarrollo de la estrategia de salud mental y participando también activamente en ese plan de acción del gobierno de españa por lo tanto es lógico el acuerdo yo creo que tendremos posibilidades en otros momentos

eta batasuna balio bat da este debate desde el punto de vista del procedimiento es conjunto según el orden del día pero no según mi esquema mental la iniciativa del señor hernández llega

mediados de septiembre señor hernández no comparto los planteamientos de su justificación pero al ir avanzando con la atención en cada uno de los puntos de su parte dispositiva voy encontrando en ellas coincidencia de ideas referencias a documentos que soportan

y me planteo como no puede ser de otra manera llegar a un acuerdo sobre esta importante cuestión y para ello nos ponemos a trabajar respetando el esquema inicial de su iniciativa

prestaciones y servicios de salud mental nos escribe señor hernández la estrategia de salud mental actualmente vigente en euskadi y los documentos técnicos del consejo asesor de salud mental utilizan

por eso en aquel momento en este momento de negociación le hemos hecho una propuesta en este sentido dos de su esquema garantizar el derecho a la autonomía de las personas con problemas de salud mental

que atiende precisamente a estas cuestiones por ello le hacemos una propuesta

específicos orientados a la prevención y a la promoción de la salud mental

y señor hernández nosotros le décimos que las medidas de promoción de la salud mental son transversales no asistenciales y atienden a cuestiones como la buena crianza el desarrollo del apego temprano

en este sentido ya se están desarrollando iniciativas en centros de salud formación e implementación de la parentalidad positiva o disminución del estrés en centros escolares programa de desarrollo

orientado a la incorporación de habilidades de manejo del estrés y aumento de la resiliencia en adolescentes no obstante es un área en la que

cuatro trabajar para eliminar la estigmatización y favorecer el bienestar social de las personas con enfermedad mental escribe bien nosotros

interinstitucional para el abordaje del estigma en la participación de todas las administraciones y agentes

y los agentes directamente concernidos por el estigma que pesa en las personas con un diagnóstico de trastorno psiquiátrico y por ello y en base a lo que

propuesta cinco mostrar su especial preocupación nos escribe por las mujeres con enfermedad mental que sufren violencia de género y a implantar medidas

de las mujeres con enfermedad mental siempre cuidando evitar la estigmatización y en base a ello le hacemos una propuesta seis implementar investigaciones para la evaluación

mentales muy interesante lo relacionado con el modelo de recuperación que se recoge en la estrategia también propuesta y así

nosotros señor hernández hemos respetado el marco de debate que usted ha establecido hemos mantenido el esquema de su iniciativa

planteaba y hemos planteado propuestas de verdadero avance en todos esos ámbitos pero bueno pues no hemos

yo como antes se comentaba espero que todo este trabajo sirva a futuro es

realizado la segunda parte decía hay dos partes tenemos la iniciativa la moción de la señora garde en la que nos desarrollaba su teoría del nuevo tiempo en salud mental teoría que se basa esencialmente

ampliar de tal manera el concepto de salud de salud mental que este se desborda sobre el concepto de estado emocional haciendo prácticamente desaparecer

ya nos dejaba meridianamente claro la sailburu en respuesta a su interpelación que son dos conceptos diferentes y que no requieren

teoría suya no es inocua su aplicación tiene efectos usted hace una lectura apocalíptica de una sociedad desprovista de recursos propios y por ello abocada a una situación de desamparo psicológico y sufrimiento en la que el sistema sanitario aparece como la única posibilidad de solución cuando esto no es cierto todas todos

para afrontar la adversidad a la que nos vemos sometidos en diferentes situaciones vitales relacionadas con experiencias traumáticas o de pérdida todas

esa es nuestra primera línea de protección que usted destruye además

contamos con redes familiares y sociales en las cuales podemos encontrar alivio y solución al malestar psicológico asociado

que su teoría también destruye cuando estas dos líneas de protección no dan total solución siempre siempre hay una cobertura en el sistema sanitario a través de atención primaria o en casos más graves de las redes de salud mental

profesional de la salud mental por lo que puedo ver que habla de su concepto el propio término de salud mental tal y como se está utilizando en estos momentos

sinónimo de cualquier estado de ánimo o emocional que no sea el de completa satisfacción muy interesante más allá de su

que también incluso en pandemia en términos generales y digo en términos generales la capacidad adaptativa de la sociedad ha sido muy elevada

desde mi percepción desde mi percepción seguramente muy básica

yo tengo una imagen de esta realidad de la que hoy debatimos que se basa en cuatro niveles de protección el personal cómo me enfrento a mis adversidades el de mi entorno cercano

a enfrentarme a esas adversidades el de la atención primaria y el de la red de salud mental con la aplicación de su teoría usted se carga el setenta y cinco por ciento de mi escudo de protección señora garde

háganos un favor a todas y todos y deje de

esa propuesta creo que estaba plagada de continuar trabajando

seguir desarrollando es decir a ver aquí está habiendo un incremento de los problemas en salud mental esto es una realidad y seguir haciendo lo que veníamos haciendo hasta ahora pues parece ser que no vale porque miren qué resultados entonces habrá que hacer algo más

con el señor hernández pues porque igual no le han propuesto nada nuevo no lo sé ya lo aclarará el señor hernández pero bueno

científica y la comunidad médica definieron qué es la salud mental no vamos nosotras aquí a definir nada ni decir qué es y qué deja de ser pero hablan del bienestar

amplio espectro no solo de enfermedad mental sino de salud mental de poder hacer frente de forma natural a todos los retos y contratiempos que nos plantea la vida y eso es la salud mental

que todo el mundo tiene herramientas y que todo el mundo tiene redes y que yo aquí vengo a decir que algo apocalíptico y alarmista

no tenemos las mismas herramientas y todas no tenemos las mismas redes a las que acudir y eso es una realidad entonces necesitamos una atención para todas

para esas personas que tienen necesitan otras necesidades y otros apoyos cuál es su propuesta cuál es

amigos a tratar sus inseguridades y sus cosas eso es lo que usted propone

gehiago eta hobeto egin behar dela sus propios informes subrayan

que la pandemia nos ha superado y que las medidas tomadas no han sido suficientes y que además la situación es estructural no coyuntural y que no solo responde a la pandemia

voy a explicar por qué entiendo yo o entiende mi grupo que no hemos llegado a un acuerdo se ha pedido por ahí a ver si era posible explicarse y además también el señor aiartza y el señor rico han hecho referencia a esa negociación

estos días bien yo desde el reconocimiento como decía antes que ha habido por ambas partes un intento de acuerdo creo que sincero desde el reconocimiento a algo que

de respetar ese marco que planteaba nuestra iniciativa original

abordar las nueve cuestiones que nosotros planteábamos en nuestra iniciativa original pero el desacuerdo luego estaba

de esas nueve iniciativas es verdad que había puntos en los que

había puntos concretos en los que yo desde luego hubiera podido firmar nuestro grupo hubiera podido firmar pero había otros que no

por eso nosotros también les trasladamos una contrapropuesta en la que incluíamos esos elementos que entendíamos que no estaban recogidos

tal vez la cuestión de fondo porque es imposible en este tiempo explicar a las parlamentarias y parlamentarios cuáles son las cuestiones de desacuerdo

es que para nosotros muchas de las cuestiones que planteábamos las planteábamos

de que se hagan porque muchas veces ya están en los papeles y en los papeles seguramente sí estamos de acuerdo y hago referencia a lo que ha dicho el señor rico sobre que compartimos

que está sobre el papel pero luego creo que todo el mundo es consciente de que día a día también constatamos diferencias en el ejercicio práctico de ese

que de lo que se trataba era de poner en este caso sobre papel cuestiones que avanzasen en el ejercicio práctico de la política en relación en este caso a la salud mental no en reiterarnos pues poco en lo que se ha dicho porque tenemos diferencias

muchos de estos puntos de continuar desarrollando o de continuar implantando etcétera pues nosotros lo que contrastamos

es que en realidad no se hacen y no era nuestro objetivo venir a hacer una crítica furibunda a las políticas del gobierno sino a proponer que se pongan en marcha esa serie de medidas que los diferentes agentes hemos hecho referencia a determinados informes importantes que tienen que ver además con los pacientes y con los familiares han puesto sobre la mesa que fallan

pero están fallando muchas de las cuestiones el señor aiartza ha hecho referencia

es que para que la iniciativa para elkarrekin podemos fuera aprobable tenía que meterle mano a esas cuestiones porque sabemos como he dicho antes que los recursos incluidos en la cartera de servicios sociales para jóvenes con enfermedad mental no se están desplegando y esa era una cuestión para nosotros importante

no había acuerdo porque estamos detectando cómo la atención es insuficiente para los menores está aquí la consejera estoy seguro de que conoce los resultados de todos esos informes

planteábamos de una manera muy específica cada vez son mayores las consultas de centros escolares en relación con los problemas de salud mental en alumnas y alumnos es verdad que se hacen cosas pero sabemos también que no todos los centros

sensibilización en salud mental y que faltan actuaciones sobre estas cuestiones que la formación de las y los profesionales en educación

en este sentido el gobierno debería actuar de manera concreta y sobre la cuestión de la violencia de las mujeres pues también nos parecía insuficiente el planteamiento que se nos hacía

con los recursos porque ya lo he dicho en mi primer punto está bien estamos de acuerdo que se aumenten los recursos en atención a la salud mental pero lo que estamos

donde pues tal vez no había acuerdo para garantizar el aumento de recursos en concreto en las redes de salud mental y para evitar también lo que nosotros pensamos que ha venido disminuyendo y que pensamos que es un error en relación con los módulos psicosociales

había elementos de acuerdo y nosotros lo valoramos positivamente y vamos a seguir trabajando porque hemos visto

de asuntos por la disposición de los grupos que apoyan al gobierno pero también hay elementos que a nosotros desde luego no nos satisfacen en relación a las demandas que entendemos que existen en estos momentos sobre lo que se debe modificar

gracias eskerrik asko presidente andrea voy a ser

pero sí que a mí me sorprende señor aiartza yo imagino que serán directrices marcadas por el gobierno obviamente son ustedes

pero sí que es cierto que me deja un poco perpleja la capacidad mínima

que obviamente es de actualidad y está ahí y yo creo que las cifras hablan por sí mismas los propios especialistas

relacionados con cuestiones de salud mental están alertando de ciertas

pero está claro que la situación actual no se puede mirar desde el prisma

que es como si no hubiéramos pasado una situación de pandemia con las consecuencias que ha traído a nivel físico a nivel

también de la salud mental como decía

claro es que caer en una depresión no es fácil caer en un trastorno

no es fácil y requiere atención por los profesionales eso es así

está muy bien que podamos tener un entorno familiar que nos pueda ayudar está muy bien

obviamente se requiere una atención por profesionales

y especialistas que están ubicados en la red de osakidetza por lo tanto no se trata de resiliencia sino se trata

personas incluso estamos hablando de cuestiones

una atención farmacológica es decir no es fácil salir como le decía

situaciones de estas y a propósito también de la pandemia y no es fácil salir de un estado depresivo una cosa yo creo que es un episodio de tristeza o de pena puntual que nos puede pasar a todos y otra cosa es lo que se dice ya caer en un proceso de depresión o de ansiedad que requiere como digo la atención de servicios

que hay personas que están en especial situación de vulnerabilidad es que hay muchas personas mayores que realmente han estado solas a lo largo de esta pandemia y hay mucha red familiar

y en las personas jóvenes también en las personas que han tenido una situación de incertidumbre por su trabajo por la posible pérdida de un empleo por la incertidumbre del futuro de qué va a pasar

por eso desde el grupo que represento nos parecía importante hacer un análisis de la situación de la salud mental y emocional

tras la pandemia poder reforzar

dirigidos a la salud mental también abordar la posible carencia de profesionales que yo creo que todos sabemos que la hay adoptar medidas en el ámbito

preventivo y de promoción de la salud para evitar

con la salud mental y por otra parte también

históricos yo creo que son medidas razonables las que proponemos por parte de nuestro grupo algunas coinciden con los otros dos grupos pero yo lamento

no se muevan un ápice en el sentido de que se mantendrán vigilantes de que ya existen recursos bueno yo creo que la situación que hemos vivido y en la que estamos ahora requiere

más profundo y desde luego adoptar aquellas medidas que puedan ser necesarias que es que es necesario adoptar medidas no se puede despachar esto diciendo que osakidetza se mantendrá

yo le reconozco que la enmienda que presentamos de origen fue la misma que en el debate de junio es verdad

valoramos la diferencia de perspectiva que planteaba elkarrekin podemos y que por eso trasladamos desde el principio la posibilidad de llegar a una transacción yo le he leído aquí el resumen no he ido a la concreción aunque he sido largo en la exposición para dejar claros los puntos había más

he leído un resumen que creo que es bastante amplio y además que creo que difícilmente algún grupo de esta cámara pueda decir que no está de acuerdo con todos y cada uno de los puntos que hemos planteado mi lamento ha sido el de no haberlo podido materializar en un texto que hoy votemos porque me gustaría ver yo le vaticino que posiblemente sería un texto en el que no hubiera ni un solo voto en contra ni un solo voto en contra

no solamente temporal porque hay un reconocimiento de que quien puso encima de la mesa en este periodo de sesiones fue elkarrekin podemos y luego eh bildu hizo el atajo a través de una moción consecuencia de interpelación

y es que vuelven a incidir en la necesidad de hacer

estudio específico voy a explicarme como si los condicionantes psicológicos fueran para todos iguales menos para la ciudadanía vasca no

y de salud mental y de salud emocional son los mismos aquí en kuala lumpur

y en burdeos y en burdeos son los mismos le vuelvo a repetir

en la posibilidad de respuesta a la ciudadanía a través de los servicios públicos que esos sí lo condiciona el ámbito geográfico donde nos haya tocado nacer o vivir claro que sí y el desarrollo de esos servicios públicos entonces ustedes siguen una vez más en no es que hay que hacer ese

de españa existen estudios hechos por diferentes

los tiramos no no no y es que además son estudios coincidentes

ver que es que los vascos en esto también somos igual que una persona de albacete aunque nos duela

por si no quiere la comparación de albacete es así a partir de ese momento lo que tenemos que hacer es poner nuestros servicios públicos en acción

acuerdo de gobierno el acuerdo de gobierno suscrito entre partido socialista y partido nacionalista vasco

sucede en un momento en el que ya ha pasado el confinamiento en el que ya contamos con las recomendaciones de los organismos internacionales en la que ya hay incluso estudios hechos y se recoge creo que literalmente igual me falla un poquito la memoria especial en la salud mental programa de gobierno que se traen meses después la nueva estrategia de salud mental de verdad eso no es moverse

de verdad eso no es moverse oiga se acuerdan y aquí hay una respuesta al partido popular creo que al señor barrio en una pregunta que se hace sobre esa en la que el departamento en la estrategia en el plan del gobierno de españa en el que se llega a decir la estrategia del año dos mil diez fue consecuencia también

mire en el plan de acción que se está planteando

se puede ver en las respuestas que se le dio por parte de la consejera se puede ver

a mí lo que me llama la atención es que exista un reconocimiento de que se está avanzando fuera de aquí y no en esta cámara y no en esta cámara yo creo que a veces en ocasiones cuando se plantea un buen acuerdo que yo creo que esto lo que habíamos planteado el señor aiartza y yo es un buen acuerdo igual es que

no lo creo no lo creo yo creo que era de verdad un buen acuerdo tan bueno que hoy nadie hubiera votado en contra

de esa iniciativa pues creo que hay que huir de los vértigos yo creo que cuando se plantea un texto que puede ser bueno para la ciudadanía vasca pues es mejor adoptarlo

votarlo que quedarnos al final en una defensa de las esencias vamos a tener tiempo

porque estamos trabajando en esto mismo y con esto acabo en diferentes ámbitos y en uno de ellos

esos mismos puntos de vista no nos tiene que costar tanto traerlos aquí nada más y gracias eskerrik asko rico jauna

eskerrik asko mahaiburu andrea un detalle primero señora garrido señora garde teoría básica de la negociación se tienen que mover los dos es que usted no se mueve es que usted no se mueve

no es estático es evidente que vamos a debatir más sobre esta cuestión y

en su teoría me parece bien lógicamente es legítimo yo también conozco

al esquema que nosotros propugnamos le voy a leer unas pequeñas notas de un escrito que seguramente también usted conocerá de profesionales

las personas tenemos más capacidad de afrontamiento y resistencia psicológica de lo que parecen asumir algunos esta estrategia para reivindicar servicios tiene consecuencias peligrosas como psiquiatrizar reacciones humanas normales convenciendo a la población de que su malestar precisa ayuda técnica

suplantando el apoyo solidario de otras personas no olvidemos que los profesionales sabemos de enfermedades de problemas graves de salud mental

y sus angustias no más que cualquier otro ciudadano en esta época incierta la responsabilidad de los profesionales y de los medios es la de dar una respuesta adecuada

en modo alguno amenazar reiteradamente con epidemias de sufrimiento psicológico que terminen de verdad desbordando los servicios de salud mental y los desvíen de sus prioridades asistenciales

yo suscribo esas palabras quiero hacer también un análisis si usted me lo permite me gustaría hacer un análisis

sobre otros elementos de su teoría del nuevo tiempo primer elemento hoy hay que hacer un profundo diagnóstico

no estuviese constantemente testándose análisis como se ha comentado análisis estudios e informes del consejo asesor de salud mental y otros y aplicando las conclusiones a su práctica asistencial pero no no hay que parar y hacer un profundo diagnóstico

segundo elemento la necesidad de ir de la mano de los agentes implicados muy importante ciertamente lo que espero es que a sus agentes implicados les trate un poco mejor que a mí no que también soy un agente implicado en esta cuestión parlamentaria y bueno

estas son mis dos líneas rojas y que lo sepáis de su iniciativa muy bien me apunto la idea me apunto la idea y aunque no sé por qué y referido a cómo les va a tratar a los agentes implicados creo que a los agentes les tratará conforme a ciertas indicaciones

utilización de datos las directrices de la oms no consigo encontrar a nadie que conozca sus directrices de la oms denos alguna pista más

presupuestarios el veintidós de junio el periódico naiz

presupuestarios recogía una entrevista que le hacen a usted titula

en él se recoge que usted considera grave que en la última década

haya descendido en un diez por ciento voy a la última década diez años dos mil doce incluido total salud mental

ciento sesenta y nueve coma siete millónes de euros compruebo toda la secuencia voy a dos mil veintiuno hoy total salud mental ciento ochenta y nueve coma nueve millónes de euros en diez años un incremento de más de veinte millónes de euros en diez años no se reduce un diez por ciento se incrementa en más de un diez por ciento pensé que

no no hay equivocación lo más grave es que usted tenía esos datos con anterioridad se los había entregado

dos semanas antes dos semanas antes en cualquier caso ya voy entendiendo qué es esto de su teoría del nuevo tiempo artificio

partidismo y datos falsos señora garde buenos cimientos para su nuevo tiempo eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna

gracias señora presidenta consejeros consejeras señorías buenos días

hace dos semanas debatíamos presentaba la señora consejera de salud una interpelación en relación con

señora darias después de un encuentro que habían tenido primer encuentro de atención primaria retos y oportunidades se llamaba en las islas canarias que había reunido a los consejeros y consejeras autonómicos de salud para abordar un debate

orientado desde luego hacia los retos de futuro de la atención primaria en españa y que lo celebraron

hubo una declaración la recordábamos en el trámite de la

donde se decía que ese plan de acción integral de atención primaria estará orientado hacia un abordaje integral de los problemas de salud más frecuentes la práctica clínica centrada en la persona y la comunidad yo creo que eso son

cuestiones desde luego que no solamente a nivel del ministerio sino ya a las propias comunidades autónomas ya se encargan

los determinantes sociales de salud la mejora de la capacidad de resolución diagnostica el fortalecimiento

tendría en cuenta el crecimiento profesional el impulso de los sistemas de información digitalización

adaptación a la formación y los recursos humanos un tema muy importante

referencia y sentido después de en el plan ese de acción de atención primaria y

pero abocados a qué a una estrategia común

autonómicas función de las competencias y lógicamente en el desarrollo ya histórico de las mismas sino un paso más un paso más en la posibilidad

de forma específica en el pleno de la comisión de recursos humanos del consejo interterritorial del sistema nacional de salud

la actualización adaptación de la formación sanitaria especializada

donde ámbitos estatales son más competentes lógicamente se aludía a las organizaciones profesionales científicas sociales políticas a trabajar también en todo esto y bueno y a prevenir la enfermedad a la mejora de la eficiencia del sistema nacional de salud donde nosotros nos integramos a dar respuestas a la actual y a las

todo esto nos ha enseñado que tenemos que estar mejor preparados que lógicamente es un ejercicio que en relación con lo que puede pasar

con una pandemia o con una crisis sanitaria de las características que sea no y el reconocimiento

no se han hecho mal que se han hecho bien que la atención primaria pues bueno pues también en españa pues es una de sus señas de identidad del sistema nacional de salud

que todas las comunidades han podido hacer en este tema no y entonces

se podía haber se podía seguir trabajando y

y eso podría formar parte de otros debates que los tendremos sin duda porque de la atención primaria tenemos que seguir hablando además por los compromisos del gobierno

que se deben producir pero en cualquier caso yo me refería en mi interpelación y ahora en mi moción al plan supraautonómico al plan de

al plan de la declaración y la moción que presenté es consecuencia de esa interpelación y que la presenté a la vista de la abstención también

de euskadi dentro del consejo interterritorial en esa cuestión nosotros por eso

independientemente de algunas valoraciones consideramos muy importante sin

discutir ni debatir el sentido de la abstención ya se explicó bueno ya

esa participación activa en la confección del plan de acción

a ese plan no impida que la participación sea activa entendemos que no también por el acuerdo que hemos alcanzado en relación con los trabajos del consejo interterritorial

y el propio la vinculación al propio plan de acción de atención primaria que esa abstención pues no impida esa participación activa nosotros la consideramos esencial

porque las competencias de la comunidad autónoma vasca están claras están clarísimas están ahí

tendrá que seguir haciéndolo nosotros ayudaremos o criticaremos

están claras pero las posibilidades de reforzar el papel de la atención primaria también están en manos del gobierno

ese reforzamiento o sea que entendemos muy importante muy interesante también comprometerse en ese ámbito

y otros que tienen que ver ámbitos estatales con la formación especializada universitaria o de los que tienen que ver con materias de seguridad social

la posibilidad de reforzar la atención primaria no solamente está en nuestras propias competencias sino

del estado es muy importante por eso aprovechar todas las oportunidades que se nos dan

posibilidades de desarrollo de nuestras propias competencias pero también como he dicho también el desarrollo de las posibilidades de actuación de las autoridades estatales en esta materia y hoy más que nunca además

nosotros hemos podido hablar con responsables de comunidades autónomas en materia de salud

en el ámbito supraautonómico en favor de la atención primaria en ámbitos de

se tendrá que hablar desde luego en la comisión de recursos del consejo interterritorial o en la elaboración del propio plan

en creación de nuevas unidades docentes flexibilización de la acreditación de centros en reforzar el papel de los tutores no digamos nada en el aumento del número de plazas de

también en el desarrollo de nuevas especialidades ahí está sobre la mesa la creación de la especialidad de urgencia para evitar el trasvase

especialidad de enfermería familiar y comunitaria y de las enfermeras pediátricas de atención primaria y definir esos puestos de trabajo es decir hay muchas cuestiones hay otras que tienen que ver también con la posibilidad de que

de españa el ministerio de salud aborde

tecnológicos de aparataje sanitario de productos sanitarios que puedan beneficiar también a las comunidades autónomas a partir de la actuación estatal en relación

la financiación pero sí el hecho de contribuir con recursos ya materiales al desarrollo también de la atención primaria o sea que en ese sentido hay mucha capacidad de actuación y está puesta sobre la mesa la homologación de los profesionales sanitarios

refuerza la atención primaria agilizar la homologación el real decreto cuatrocientos cincuenta y nueve barra dos mil diez que regula las condiciones el real decreto

y plantear esas cuestiones o facilitar ámbitos de desburocratización se habla también en relación con lo que habla de los médicos de familia pues pedir

la incapacidad temporal o suprimir de la normativa la obligatoriedad de que sea el médico el que firme todo tipo de informes de salud si hay profesionales de otras categorías cualificados para hacerlo

de las que se puede hablar de las que se puede hablar para reforzar desde luego la atención primaria muchas cuestiones y que no dependen de nuestras solas únicas competencias sino que

otras administraciones y en ese sentido era nuestra moción es

se puede trabajar también activamente en la elaboración de ese plan de acción específico sobre atención primaria hemos presentado

ellos presentaban una enmienda de totalidad lógicamente haciendo mención a lo que yo también hacía al ámbito competencial

la actividad propia del plan de atención primaria propio lógicamente es importante y hay que desarrollarlo hay que cumplirlo y hay que elaborar uno nuevo cuando

potente y con las lecciones aprendidas pero también desde luego la participación activa del departamento lógicamente en el seno del consejo interterritorial y incluido este plan de acción específico sobre atención primaria

de plazas de especialidad de medicina familiar y comunitaria algo que

de nuevas especialidades yo termino

en las enmiendas las enmiendas son interesantes

y el grupo elkarrekin podemos aunque forman parte más del debate de nuestras propias competencias

y otro en el ámbito del desarrollo de la atención primaria y de la señora ubera

el veinticinco por ciento del gasto sanitario pues ahí están los presupuestos efectivamente ahora

donde todos nosotros desde la oposición trataremos de reforzar también el gasto sanitario en atención primaria o sea que está bien el planteamiento que lógicamente nosotros queríamos referirnos al plan español

al plan de acción de atención primaria anunciado en esa declaración sobre atención primaria

ubera pues atendiendo a las necesidades internas de la atención primaria a la identificación de los problemas de las

fruto de un debate ya general lógicamente que se ha planteado que ustedes también han debatido sobre el tema pero vuelvo a decir

de esa declaración de los departamentos de salud de las comunidades autónomas y que pueda dar frutos muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

de ámbito competencial vasco pero también hacíamos referencia a cuestiones de ámbito competencial estatal y a cuestiones que se han tratado

consejo interterritorial y en esa cumbre de la que se sacaron unas determinadas conclusiones pero bueno no hemos hablado no hemos transaccionado nosotros estábamos un poco despistados con su iniciativa original porque pensábamos que

al gobierno vasco que participase en ese consejo interterritorial que entendemos que participa y por lo tanto nosotros incluimos

no ha habido negociación nosotros con el acuerdo al que han llegado del que nosotros no hemos participado nos ha informado esta mañana no tenemos especiales pegas

con las conclusiones de ese consejo interterritorial es cierto que formamos parte del gobierno en el anterior debate se ha hecho referencia a que el partido socialista y nosotros

lo que no quiere decir que tengamos diferencias concretas y en este caso en esta materia las tenemos y estamos muy atentos a la opinión crítica que han sacado las federaciones de defensa de la sanidad pública a nivel estatal y por lo tanto pensamos que lo que le falta coincidimos con ellos con ese tipo de declaraciones es llevar a la práctica las cuestiones

lo que también hemos debatido en el debate anterior porque algunas de las cuestiones

estratégico para la atención primaria y comunitaria estatal hablo estaban también en las conclusiones de la comisión de

nosotros estamos de acuerdo en el planteamiento de aumento de plazas de la especialidad de medicina familiar y comunitaria la convocatoria

también estamos de acuerdo en la creación de nuevas especialidades lo planteábamos en la enmienda que hemos presentado a su iniciativa por lo tanto esta es la explicación por la que nosotros vamos a vamos a abstenernos a

gracias señora presidenta en primer lugar yo voy a advertir me voy a centrar principalmente en la cuestión que se ha planteado para el debate por el grupo proponente que no es otra que la participación del departamento de salud del gobierno vasco en la confección del plan de acción específico sobre atención primaria publicitado por el ministerio de sanidad en el seno del consejo interterritorial del sistema nacional de salud porque luego ha habido otros grupos que a través de sus enmiendas

como puede ser el punto dos de la enmienda de elkarrekin podemos o el total de la enmienda de

y no es que no quiera debatir sino que ya hemos debatido sobre lo que vuelven a proponer en esas enmiendas y ya hay acuerdos adoptados por una amplia mayoría de este

la mejora continuada de la atención primaria en euskadi porque lo que allí recogen hoy podemos y eh bildu es lo mismo que han venido planteando ustedes en otros debates entre otros en la moción consecuencia de interpelación de eh bildu de medidas para hacer frente a la atención primaria y debatida el once de noviembre de dos mil veinte

en colaboración con personas expertas experimentadas y agentes del sector que debatimos el pasado veinte de mayo y les decía que además de haber debatido

de once de noviembre de dos mil veinte en relación a las medidas a adoptar en atención primaria un texto que presentamos partido socialista y partido nacionalista vasco de dos puntos uno referido al contexto de la pandemia y otro con carácter general con catorce compromisos concretos

ninguna locura ni mal porque no hubo ni un solo voto en contra ni un solo voto en contra de esta enmienda por lo tanto en cuanto a las cuestiones que han planteado eh bildu y podemos en esas enmiendas que no son la cuestión que

y acuerdos que ya hemos tenido y adoptado en este parlamento para mejorar la atención primaria en euskadi que es un objetivo que los socialistas y este gobierno comparte y en lo que estamos con una hoja de ruta clara a la que se suman también

interterritorial de salud que precisamente se elaboró también con la participación y aportaciones del departamento de salud del gobierno vasco

líneas estratégicas y treinta y cinco acciones concretas a partir de ahí y volviendo al asunto planteado por el partido popular pues como entenderán

que las instituciones trabajen de forma conjunta en el ámbito de sus competencias para ofrecer la respuesta más completa a los ciudadanos y ciudadanas

la atención primaria es el eslabón básico de promoción y defensa de la salud y atención sanitaria y nos encontramos con una escasez de profesionales de medicina

salud comunitaria y yo creo que la apuesta realizada por el ministerio de sanidad de promover en el seno del consejo interterritorial de salud el primer encuentro de atención primaria fue un acierto como es un acierto que el departamento de salud del gobierno vasco haya participado en el aportando su experiencia

es en el que hemos planteado la enmienda suscrita por partido socialista y partido nacionalista vasco que nos ha llevado

con el grupo popular en la que sobre la base del respeto del ámbito competencial propio y la defensa del plan sobre atención primaria definida y explicado al comienzo de legislatura

valoramos la participación activa del departamento en el seno del consejo interterritorial del sistema nacional de salud y en sus comisiones en los diferentes temas que trate incluido

así como la creación de nuevas especialidades tal y como por cierto se está haciendo desde el ministerio de salud

las serias dificultades con las que nos encontramos para los relevos en estas plazas no son achacables ni a la administración de euskadi ni al resto de comunidades autónomas o al actual ministerio de salud

tal y como ha informado el ministerio de sanidad recientemente en la convocatoria actual dos mil veintiuno dos mil veintidós

acreditadas en la especialidad asimismo el pasado trece de octubre el ministerio sacó a consulta pública previa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

y respecto a nuevas especialidades pues hay que seguir avanzando y en eso estamos

de ya tener prevista la creación de la especialidad de psiquiatría infantil y de la adolescencia algo que por cierto

así como la incorporación de la medicina legal y forense creo que es una buena noticia que se haya anunciado por la ministra darias que sanidad fija en el primer trimestre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

que estimará las necesidades de sanitarios ante las jubilaciones que se prevén

yo creo que eso es lo que valoran los ciudadanos y ciudadanas que entre todos dentro de las competencias que cada uno tiene asumidas nos pongamos a remar todos en la misma dirección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

eguerdi on guztioi señor barrio

escuchó una respuesta extensa nítida clara cristalina y ha vuelto a las dos semanas para insistir en el pleno

que básicamente copia nuestra enmienda y añade una demanda que ya hizo la consejera es decir

y aunque nos hemos reiterado vamos a la cuestión miren

ya lo ha dicho el señor rico en octubre del dos mil veinte la consejera de salud nos explicó su plan de acción para la legislatura y nos dijo que entre otras cosas el reforzamiento de la atención primaria era uno de sus principales objetivos

se presentó una moción sobre la que alguna parlamentaria le parecía una grave crisis de la atención primaria y en aquel debate presentamos una enmienda que también lo ha dicho el señor rico que resumía en una larga lista de proyectos los compromisos

todos los grupos se abstuvieron es decir no mostraron ninguna disconformidad con que eso era lo que había que hacer en materia de atención primaria

o alguno otro menos que de todo hay en la viña del señor pero tristes

y por tanto el gobierno además mantiene sus proyectos para esta legislatura en materia de atención primaria sabiendo que nadie se opone a ellos nadie

aunque esta vez se añadía que se haga de la mano de otros de las demás comunidades autónomas y del ministerio y miren no y mil veces no la competencia es de este país de sus ciudadanos de su gobierno y de su parlamento como ya dijo

que a mí ya no se me ocurre nada nuevo colaborar y cooperar lo que quieran aprender y enseñar

intercambiar sin ningún problema pero elaborar para asumir sin más un plan

pues no y nosotros entendemos que de ahí vienen sus abstenciones continuas

la diferencia entre su propuesta inicial señor barrio y la nuestra es que usted instaba a participar y nosotros entendemos que participe

este parlamento no debe instar al gobierno a participar en reuniones con terceros quiénes somos nosotros para decirle al gobierno

sobre todo si las reuniones son para hablar de competencias propias

nosotros y por lo que el otro día dijo la sailburu también el departamento de salud el modelo de consejos interterritoriales y aquí voy a intentar generalizar

es un modelo que inicialmente tenía muy buenas intenciones

coordinar cooperar pero paulatinamente se ha ido convirtiendo en un modelo en el que las mayorías deciden hacer las cosas forzando directa

a todos a actuar de un modo homogéneo quebrando las capacidades y las competencias propias no es muy lejano el tiempo en que por ejemplo

hasta ahí muy bien pero la conclusión a la que llega que como mucho puede ser una recomendación

se convirtió prácticamente en una obligación que terminó por llevar a un magistrado a apoyarse en tal recomendación

en función a su competencia sí a los consejos territoriales siempre que se trate de intercambiar información y experiencia

a los consejos interterritoriales siempre que se trate de cooperar de colaborar en proyectos comunes y de mejorar el sistema de salud o el sistema que usted quiera pero no al consejo interterritorial si pretende que sus decisiones se conviertan en lijas que devastan nuestras competencias si uno

observa que el consejo interterritorial se compromete a elaborar un plan de acción sobre atención primaria lo que no está mal si se tratara de un mero ejercicio de intercambio de información de aportaciones técnicas o intelectuales pero en ningún sitio pone cómo se va a hacer ni qué significa e implica

en ningún sitio y si la competencia en atención primaria es de este país qué hacemos después con las conclusiones a las que

quiere que se llegue en materias como práctica clínica capacidad de resolución diagnóstica crecimiento profesional sistemas de digitalización fomento de la

todas ellas de competencia exclusiva de euskadi claro que hay algún tema que depende del ministerio como el de la falta de profesionales en formación ante la posible avalancha de jubilaciones pero para eso ni siquiera hace falta una reunión eso ya lo saben todos

si hay escasez de profesionales de atención primaria no lo es precisamente porque este ministerio no haya sido previsor lo es porque no lo fueron los anteriores y en cualquier caso por eso hemos aceptado y hemos añadido ese aspecto a la transacción de ahí nuestra enmienda que ha quedado intacta en la transacción y que viene a resumir la que antes le he comentado de noviembre del pasado año que desglosaba uno por uno todos los compromisos adquiridos por el departamento en octubre del dos mil veinte

en su globalidad a la hora de ir al consejo interterritorial de salud y apostando por que se participe siempre defendiendo las materias de las que somos competentes evitando intromisiones y sobre todo no instando al gobierno a participar en un consejo interterritorial

que ya sabrá el gobierno lo que debe de hacer para desarrollar sus competencias y compromisos de legislatura sino entendiendo que asista al mismo para intercambiar

por eso le señalamos al departamento de salud que entendemos como lógica su participación que creemos que es bueno aprender enseñar e intercambiar

en una nueva intromisión competencial en un nuevo lijado de nuestras competencias y sin más agradezco el esfuerzo de transacción que concluye en una resolución que nadie ponga en duda es de sentido común

iniciativas que firmo lo hago cuando son lógicas razonables y de sentido común pero en este caso y en todos los demás yo intento que así sea y por eso he presentado la moción

he entendido desde el mismo instante que mantuve la interpelación yo pensé que había un ámbito de encuentro y de actuación y por eso lo he estimulado bien la señora ubera ha dicho que si no participásemos algo así como que no

sería negativo sería negativo para nosotros porque no tomaríamos parte en la toma de decisiones que nos puede afectar

en desarrollo de la atención primaria que hay muchos ámbitos que son muchos o algunos ámbitos que son que pueden ser competencia del gobierno central como hemos visto

sí que sería negativo y usted ha dicho que es más que coordinación

es una actuación conjunta una implementación de medidas lo que se pueden tomar lo que se pueden hacer estamos hablando de las medidas de formación o de otro tipo de medidas en relación con estas cuestiones yo creo que además algunas comunidades autónomas lo han entendido bien porque hemos visto además no del signo

de otros que han entendido que este debate es importante ya han hecho referencia antes me he referido al planteamiento

una serie de cuestiones que no afectan a las competencias autonómicas están aquí mismo y no afectan a las competencias autonómicas afectan a las competencias del estado que

y el papel de la burocracia el papel de los médicos el papel del sistema nacional de seguridad social o sea que hay algunas cuestiones que está bien o sea

y por eso hay que participar porque son identificación de necesidades de un ámbito supraautonómico que algunas están ahí por eso mismo yo me quedo contento porque bueno señor tellería parece

no sé es poco importante poco relevante no yo me quedo contento porque esta iniciativa nos va a seguir permitiendo saber de primera mano porque si no participamos

vamos a saber qué ideas plantea el gobierno vasco en relación

qué posibilidades hay cómo se en coordinación eso sí en colaboración con otras comunidades autónomas y yo creo que yo hice

la iniciativa la interpelación primero pues porque no voy a decir que me alarmó porque ya había algunos argumentos

abstención cuando parece que había una mayoría clara en relación con que eso podía ser positivo bueno ya se ha explicado que la participación va a estar ahí la hemos garantizado además

y además poniendo el impulso a que eso sea así además entendiendo que eso sea razonable yo estoy satisfecho

preguntaremos lógicamente cuál es el desarrollo de ese plan porque parece

si se comparte o si no se comparte y si hay algo beneficioso de verdad para nuestra atención primaria pero yo creo que lo que he hecho es tratar de ser proactivo

a este acuerdo que hemos llegado puede ser de una redacción o de otra

sin embargo sí que creo que hemos despejado alguna duda en relación con estas cuestiones

agradezco desde luego la firma del acuerdo yo creo que es de sentido común y claro efectivamente eskerrik asko

momento delicado yo creo que lo sabemos desde hace bastante tiempo desde que una pandemia que nadie esperaba llegó a nuestras vidas e hizo que la normalidad asistencial en el ámbito sanitario

fuera del todo menos normal eso es lo que nos llevó por ejemplo al grupo socialista y al grupo nacionalista vasco a abordar

cuando tuvimos la oportunidad de buscar un acuerdo para gobernar euskadi en un escenario que yo creo que es el más difícil que nos ha tocado gobernar a cualquier institución en los

del empleo y con esa premisa fuimos el problema es que aquí ha habido grupos que han querido venderle a la ciudadanía que la anormalidad asistencial era culpa de los gobiernos

aquí ha habido grupos que han querido trasladar una y otra vez que si un ciudadano no podía acudir a una revisión o no podía acudir a su médico de atención primaria era porque desde el gobierno se estaban haciendo recortes intentando obviar lo que pasaba

en el resto de comunidades autónomas donde algunos de los partidos que han dicho eso también gobiernan también gobiernan y lo que pasaba en otros ámbitos bien

estamos en la recuperación de la normalidad asistencial en la medida de lo posible digámoslo todo digámoslo todo porque es que es muy fácil venir a este parlamento a en cada ámbito decir que lo malo

ni una cosa ni la otra hemos tenido una situación de anormalidad en la prestación de los servicios públicos por supuesto

por supuesto es que sería ridículo que yo subiera aquí a decir que no claro que sí pero tan ridículo sería eso

que todo eso ha sido culpa de que el gobierno vasco o el gobierno que sea no ha sido previsor ese es el problema ese es el problema que yo no subo aquí a decir ese tipo de cuestiones pues porque me parecen ridículas

ha sido una de las más tocadas en este ámbito de la pandemia y hay que hablar con normalidad sobre ello y ustedes creen

no estamos al cien por ciento en ese ámbito ustedes de verdad creen que cualquier ciudadano va a creer que nuestro objetivo es que esto vaya mal pues no es que a mí me parece

de perogrullo pero es que ese no era el debate además

el debate y una votación y aquí trajimos dos puntos con una serie de medidas luego desplegadas concretas

voto en contra ningún voto en contra con cómo teníamos que recuperar la atención primaria ningún en contra y eso es lo que ha venido implementando el gobierno ahora está mal ahora seguir esa hoja de ruta que nadie votó en contra en este parlamento está mal qué vamos a la ocurrencia del minuto

yo es que en ese ámbito no acabo de entenderlo

con seriedad y a mí sí me parece muy importante me parece

que el gobierno vasco que el gobierno de españa y que el gobierno de todas las comunidades autónomas vayan en esto de la mano por supuesto que cada uno en la defensa de su ámbito competencial por supuesto por supuesto también hay que hablarlo con naturalidad sin problema pero todos juntos de la mano

que no que no que esa no es ninguna solución mágica por mucho que haya grupos que salen

a decirlo no es verdad no somos tan diferentes no

como tales en esto tenemos que ir de la mano como en muchas otras cosas porque lo que está esperando la ciudadanía es que le demos respuestas

y completas completas y cuando tiene un ámbito competencial una institución es que otro tiene otro ámbito competencial y solamente alineándolo podremos dar esa respuesta completa por lo tanto yo señor barrio me felicito del acuerdo al que hemos llegado creo que es un buen acuerdo para la ciudadanía creo que todos los

ámbitos institucionales es bueno y además creo que tenemos que seguir avanzando en esos niveles de especializaciones en el ámbito que es lo que se recoge en la enmienda nada más y gracias

simplemente nosotros hemos transaccionado con el partido popular que es el único que nos ha llamado para

y sí quería por lo menos dar una explicación del sentido de voto al resto de enmiendas sin reprochar nada pero señor hernández vamos a votarle que no

porque no solo insta que hemos dicho que no somos partidarios de instar porque el gobierno decidirá lo que quiere hacer sino que además le dice al gobierno

el criterio será en cualquier caso vaya como vaya irá con el criterio que tiene que no es otro que el que

y que luego se ratificó en pleno de este parlamento el criterio de la atención primaria y señora ubera ha hecho un mix

aprovechando que el deba pasa por bergara y le ha metido con

el fondo ni siquiera dice lo que hay que hacer

dice en una de sus nuevas ocurrencias cómo quiere que se diseñe lo que hay que hacer vuelvo a repetirle lo que hay que hacer

el gobierno nos lo trajo aquí en octubre y lo que hay que hacer vino el gobierno aquí y usted presentó una enmienda una

este parlamento es el que tiene que decirle al gobierno en última instancia aunque y lo único que le dijimos al gobierno es lo que usted ha dicho que va a hacer

porque también ha dicho que hombre que ustedes están para colaborar para cooperar y hombre le he mirado

pero estaba despierto digo jolín esto está cambiando pero

y luego ha dicho que quiere una atención primaria como la que se conocía antes

y le he visto aquí nueve años no es mucho antes no sé cuánto antes

todo lo que hace el departamento de sanidad o el de salud todo

hablar con la consejera y decirle qué de antes hay que recuperar la atención primaria solo terminaré con lo siguiente hoy otra vez ha salido un estudio de opinión de la sociedad vasca de la ciudadanía no de un parlamentario o de treinta de los ciudadanos que han valorado a osakidetza en un siete coma cinco

buenos días hoy nos hemos levantado con dos noticias muy importantes el lehendakari aboga por tejer con discreción un pacto educativo que refuerce

como clave de nuestra educación y por otro lado otra noticia

impone el euskera en las policías locales esto es lo que ha salido en prensa

euskera a pesar de que hasta los tribunales consideran discriminatorias del castellano las exigencias y los perfiles que se necesitan para casi todo lo que se plantean euskera también para evitar que se cuelen ultraderechistas y españoles en nuestra policía

deducimos todo aquel que no hable euskera es de ultraderecha

desde hace décadas la promoción del uso del euskera ha sido una de las líneas vertebradoras de la acción del gobierno vasco una de las señas de identidad del nacionalismo e independentismo vascos desde aquellos últimos años de la década de los setenta incluso antes

un planteamiento que mantienen vigente en la actualidad después de años de promoción de modelos educativos solo en euskera de desmesuradas exigencias de perfiles lingüísticos en ofertas públicas de empleo de inversión en discriminación positiva de la lengua vasca de gasto público en euskaldunización de toda la población y también de subvenciones a medios de comunicación para el uso de esta lengua

en torno al euskera como si fuera una lengua reprimida víctima de agresiones externas de una sociedad que según nos venden

falseamos la realidad y así justificamos cualquier tipo de acción para la promoción del euskera la estrategia es muy sencilla victimismo sostenido en el tiempo

el grupo proponente llegaba a reivindicar para la lengua vasca políticas similares a las desarrolladas para luchar contra la desigualdad entre hombres y mujeres

ingentes cantidades de dinero invertidas por este gobierno en el fomento de una determinada lengua y resistencia social por otro lado absolutamente natural a dicha imposición cambien la estrategia y utilicen el por favor sí por la fuerza no las empresas como es lógico persiguen su propio beneficio hacer negocio

y si entienden que su idioma es el español será porque no ven posibilidad de negocio en euskera

los medios de comunicación son empresas todas privadas salvo e i te be que es un ente al servicio del poder para ser más concretos al servicio del nacionalismo vasco y que se lleva casi la mitad del presupuesto de todo el departamento de cultura hablamos de ciento sesenta y uno millónes de euros para el próximo año dinero de todos para beneficio de unos cuantos y como empresas que son los medios de comunicación deciden cuáles son sus contenidos

el idioma con el que se relacionan con la población y pese a los reiterados esfuerzos de este gobierno y de los anteriores incluido el del partido socialista los de mayor tirada

son aquellos que publican y emiten fundamentalmente en castellano es así pese a la inyección de ingentes cantidades de dinero para la consolidación de medios de comunicación

dos coma tres millónes de euros para un diario concreto como es berria con una apuesta ideológica además muy concreta como todos sabemos muy bien solo en el ejercicio en curso se inyectan seis coma cinco millónes de euros para subvencionar medios de comunicación en euskera

nulo como todos podemos comprobar señores del grupo popular ciudadanos después de cuarenta años de fallida política lingüística y de desmesurado gasto de dinero público en un proyecto ya fracasado no se trata solo de reducir las partidas por ser desmesuradas hay que eliminarlas hay que eliminarlas de los presupuestos de la comunidad autónoma vasca por ser innecesarias

y además no necesariamente afines para engordar las cuentas de los que tienen una vinculación clara y nítida con el principal partido de gobierno no se puede defender

y me sorprende que ni siquiera hayan intentado llegar a un acuerdo con nosotros porque íbamos muy en la línea en fin el cordón antidemocrático a vox propicia este tipo de situaciones

o un partido como el de los nacionalistas vascos que a través de ayudas de este tipo no tienen reparo alguno en inyectar dinero por nada a medios de comunicación que además escriben en sabin etxea año dos mil veinte hagamos un repaso reparto de los novecientos mil euros destinados a la promoción del uso del euskera en medios de comunicación que sobretodo utilizan el castellano

destino grupo noticias esa brunete mediática del pnv

claro hay que mantener también contento al principal grupo de comunicación en euskadi

y a lo largo de los años hemos estado investigando y efectivamente se han repartido

económica lo que es evidente repito es que la información en euskadi se difunde en castellano las personas que estamos en el país vasco consumimos mayoritariamente

incluyo una noticia aquí y otra allá siempre de escasa relevancia y dirigidas a un público reducido y recibo una subvención que sin ser determinante sí que nos da una situación de mejora también los partidos del gobierno se benefician de esto en especial obviamente

una política muy suya y muy de ellos es curioso que quienes promueven este tipo de subvenciones sean quienes se presentan en sociedad como adalides de la libertad de expresión y de la imparcialidad es una muestra más del circo absurdo en el que se está convirtiendo el ejercicio de la política mejor que la verdad la ficción es más interesante que la realidad debates sin sentido contaminados por postulados inútiles y falaces de lo políticamente correcto monólogos insoportables arrollados por un gobierno con mayoría absoluta que vende muy bien además la disposición al diálogo desde su convicción de que la única razón que existe es la suya si realmente se apostase en este parlamento por la prensa libre por la imparcialidad y por el contraste de versiones y posiciones dejarían a los medios de comunicación hacer sus apuestas

y no penalizando a los afines como es lo que hacen estas ayudas no tienen sentido

hemos demostrado y se ha visto que es absolutamente inútil para la promoción del uso del euskera y lo mismo sucede con aquellas que se destinan para la normalización de berria y de otros medios de comunicación en euskera es una línea de subvenciones que debería desaparecer de los presupuestos porque las pagamos todos los vascos

millones de euros a los que se pueden dar infinidad de usos y además realmente interesantes para la ciudadanía para atender necesidades y resolver problemas reales y no ficticios

y permítanme un apunte antes de ceder el paso al silencio de los partidos del cordón demócrata

un ente que debería ser de todos y que se utiliza desde hace décadas como medio para la difusión de propaganda nacionalista nunca socialista señores del psoe no se equivoquen se lleva la mitad del presupuesto de cultura repito ciento sesenta y uno millónes de euros

la programación en euskera la que además cada año se hunde un poco más y la que no despierta interés alguno a época actual la conclusión de esta forma es obvia la política lingüística de los sucesivos gobiernos nacionalistas ha sido un absoluto fracaso

este gobierno y los partidos que lo conforman utilizan los fondos destinados a promoción del uso del euskera en los presupuestos de la comunidad autónoma vasca para engordar estómagos amigos para premiar a sus medios y para intentar condicionar a los que no son de su cuerda eso es lo que hay eso es lo que creemos todos y además muchas de las personas aquí presentes sabemos que eso es cierto

señora martínez usted es la que ha firmado la moción o sea si quería usted

llegar a algún acuerdo es el que trata de buscar eso porque yo no estaba de acuerdo con su iniciativa y he hecho mi enmienda entonces usted quería acercarse a mí lo tenía hecho usted así que no nos acuse a nosotros de eso porque ya sabe

era su iniciativa es muy complicado aprobar su iniciativa

porque a través de una moción no se puede pedir que se incumplan las leyes las que nos gustan y las que no nos gustan pero a través de una moción

que no se den las subvenciones que están establecidas

virtualidad no podría ser aplicada porque hay una ley que permite

y desde luego tampoco en otro sentido no compartimos su iniciativa porque

desde luego ese criterio con el que usted plantea las cuestiones ese criterio complicaría las cosas en relación con

nosotros queremos ser proactivos con el euskera queremos ser realistas también y queremos entender que

que sí que pueden hacer un esfuerzo y tienen derecho también a compartir una determinada capacidad de informar

en castellano en euskera y a veces pues hay dificultades para hacerlo en euskera o sea que

su negativa y ya le digo si se aprueban los presupuestos será difícil que no haya convocatorias de subvenciones así que en ese sentido pues esa es una posición yo creo que complica mucho su

sabemos también sabemos y lo que criticamos nuestra posición con las políticas lingüísticas del gobierno vasco ha sido históricamente crítica

hemos entendido que hay un desmesurado uso de recursos en muchos ámbitos y nosotros lo hemos llevado

con leyes diversas o con iniciativas de otros grupos parlamentarios donde manifestamos nuestra posición pero nosotros también sabemos que

con el euskera con su fomento con su uso con su desarrollo y con su vinculación a la ciudadanía en diferentes órdenes y en este tema en los medios de comunicación pues tampoco nos parece mal

nos parecen mal las subvenciones clientelares porque sabemos que hay subvenciones

clientelares pero otras no otras son profesionales u otras son de necesidades o sea que en ese sentido criticamos desde luego las que vemos ese carácter clientelar o ideológico o subvencionador

lo hemos hecho en alguna ocasión nosotros no estamos de acuerdo con la política lingüística del gobierno vasco y en muchas ocasiones lo hemos puesto de manifiesto en muchas actuaciones pero tampoco podemos estar de acuerdo desde que usted presenta nuestro planteamiento en presupuestos será el que será ahora llegan los presupuestos haremos enmiendas

entre ellos sí que algunos que afectan a las subvenciones a medios de comunicación

con las necesidades con el volumen de difusión de esos medios de comunicación que sí que consideramos que hay un sobrexceso una sobrefinanciación un gasto desmesurado ese es nuestro planteamiento es decir consideramos que hay y por eso hemos hecho una enmienda que lo que pide es en próximos ejercicios

en esas partidas presupuestarias dentro de las subvenciones que da el gobierno dentro de las partidas que

vasco en política lingüística y en relación con los medios de comunicación y con una sobredimensión de partidas y de dineros y de millónes de euros pero eso consideramos que es así es realista lo que nosotros hacemos

gracias señora presidenta señor barrio estoy en parte de acuerdo con usted usted cree que si

como usted dice proactiva hubiera sido valorada por el resto verdad que no si da igual lo que diga vox entonces no tiene mucho sentido justificar lo que usted ha justificado sí que es cierto que usted habla de que hay que mantenerse afín a lo que dice la ley y en eso estoy de acuerdo con usted

pero bueno por ejemplo en el proceso de normalización política lingüística de la administración vasca ustedes vieron la ilegalidad de esa ley ustedes que abogan por esa legalidad

por ejemplo bueno sí denunciaron en parte pero luego regularon porque había que mantener a rajoy en el asiento dicho esto vuelvo a lo que he venido euskera homenajes a etarras unidad territorial símbolos nacionalistas esas son las iniciativas que vox ha traído a este parlamento entre otras muchas cómo las ven

como podría llevar cualquier otro grupo pero que no han llegado más allá por qué porque son de vox y todo da igual

más llamativo dan igual esas sospechosas alianzas para silenciar a vox alianzas que además deberían sonrojar a este partido socialista que nadie sabe ya si sube o si baja

contribuyendo además a su vergonzoso blanqueamiento de su pasado de complicidad con la actividad criminal de eta

un gasto superfluo y son ustedes mismos la prueba de ello aquí se debate solo

les da la gana son los mismos que hacen uso partidista de la mesa del parlamento vasco de la junta de portavoces

de diálogo de disposición al diálogo lo que hacen ustedes señores es hacer propaganda de su falsa superioridad ética y moral y digo falsa

voy a resumir lo que he dicho en mi primera intervención que creo que es justo no a las subvenciones a los medios de comunicación para la promoción del uso del euskera no

no al pago de favores a medios amigos y señores del pp repito no a la lluvia de millónes para la consolidación y normalización de medios de comunicación son empresas privadas y su presente y futuro ha de depender de sus planes de negocio como el resto de las empresas privadas de sus apuestas y sus decisiones no del dinero público que una administración interesada les inyecta yo creo que esto es lo que pedimos cuando tenemos un negocio la apuesta es nuestra no podemos depender de esas ayudas del gobierno vasco en este caso sobre todo cuando son inyecciones económicas
motivadas con un fin el de controlar los medios de comunicación que es donde saben que está su fuerza muchas gracias eskerrik asko

euskal talde popular ciudadanos taldearen izenean barrio jauna bertatik sí gracias presidenta brevísimamente

intervención ya he fijado la posición de mi grupo sí nos parecen desmesurados algunos gastos en

ejercicios presupuestarios es decir con nuestras enmiendas y luego se aprueba lo que se aprueba y lógicamente pues eso y es lo que inviable

martínez pero sí que hemos calificado de desmesurados algunos gastos lo que sí que comparto con usted señora

es el desprecio con que le tratan y la denuncia a ese desprecio del cordón sanitario que se aplica en este parlamento o sea no se puede hablar en este parlamento de las subvenciones al euskera si y sí se puede hablar de que se vaya la policía y la guardia civil

me parece una desproporción inasumible en democracia muchas gracias eskerrik asko barrio jauna eztabaida amaituta bozketan jarriko dugu